los avances conseguidos en materias como la ciberseguridad la expansión de internet la

o la inteligencia artificial van a tener influencia en todos los sectores de euskadi

finanzas y servicios y también en la gobernanza en cómo gestionamos en cómo nos relacionaríamos con la ciudadanía y en definitiva en cómo afrontamos

que tenemos como sociedad en euskadi es por eso que teniendo en cuenta que la gestión la valorización y la

lo que hoy queríamos saber es qué acciones o qué proyectos está llevando a cabo el gobierno vasco en esta materia

políticas que se manifiestan en diferentes ámbitos en el ámbito de la seguridad y la protección de los datos de carácter personal pero no solo los de carácter personal políticas que se proyectan también en el ámbito de la calidad de los datos porque no cabe imaginar servicios de calidad sin datos de calidad

a incorporar los datos a entornos o a ecosistemas que generen valor en los servicios públicos de cara a la ciudadanía por lo que respecta

este es un dato incuestionable y por tanto su gestión y su utilización por parte de las administraciones públicas solo se puede producir previa autorización de

y para los específicos fines para los que fueron cedidos a la administración en este sentido

europeo vigente en el ámbito de la protección de datos el gobierno primero a registrado ya más de ochocientos registros más de ochocientos tratamientos diferentes de datos

institucional que exige europa para la protección y la articulación de este conjunto de datos la delegada de protección de datos los responsables de tratamiento hasta ciento doce en el conjunto de sector público

etcétera etcétera y además para ofrecer seguridad y confianza en la custodia de estos datos lo cual es fundamental no solamente para los de carácter personal hace ya años que hemos

de convergencia de infraestructuras de data center que asegure la disponibilidad veinticuatro por siete de todos los sistemas informáticos con sistemas de continuidad

internacionalmente por lo que se refiere a la calidad los datos

y en este sentido tenemos el portal web mejor nutrido de los catálogos que existen entre las comunidades autónomas del estado español tres mil cuatrocientos cuarenta y uno conjunto de datos procedentes del sector publico autonómico exclusivamente

y además se incorporan a un ecosistema de generación de valor en este momento la administración que más interopera con el resto de las administraciones públicas

español es la comunidad autónoma de euskadi con interacciones

de veintitrés millónes que se llevan a cabo en el conjunto del estado español es decir el

cuatro coma siete por ciento de la población lleva a cabo el dieciséis por ciento de las transmisiones de datos entre administraciones públicas lo cual representa una proporción importantísima y es la mayor del estado español bueno todo esto pone de manifiesto que efectivamente el gobierno vasco está firmemente comprometido en la gestión del dato que es clave para el desarrollo digital del futuro

desde el punto de vista de la seguridad de la calidad y de la generación de valor que son los elementos fundamentales en esa generación y

pues señor lehendakari como usted bien ha mencionado yo estaba presente y pude escuchar cómo de forma clara usted decía

y que de forma premeditada estaba escenificando un conflicto cuando en realidad si ya lo tenía predeterminado antes de sentarse a la mesa de negociación se supone que tenía un interés distinto al que expresamente está manifestando por lo tanto usted estaba explicando

lo que usted dijo en ese momento a euskal herria bildu

es siempre una consecuencia es la consecuencia de la justicia social

si la alternativa que se nos presenta es tragar o luchar

en el conflicto del metal nosotros tenemos muy claro quién tiene razón y quién no una patronal que ha acumulado

y que no quiere ahora negociar un convenio digno no tiene razón los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho y la obligación porque la patronal con su cerrazón no les da otra opción de manifestarse hacer huelgas y salir a la calle y el gobierno debe estar a nuestro entender con quién tiene la razón

y luego aplaudir a los que no generan trabajo decente porque si hay trabajo que no es decente de quién es la responsabilidad

siempre siempre la patronal silva y ustedes expulsan o no admiten a las cooperativas en el consejo de lanbide ustedes hicieron un acuerdo de empleo que era prácticamente la externalización de los servicios de empleo la externalización de lanbide depositando en la patronal esa responsabilidad yo no le voy a pedir a usted que rectifique sus palabras

ahora está mucho más clara para todo el mundo yo sí voy a pedir que rectifiquen a los trabajadores y trabajadoras que todavía tienen la esperanza de que con un gobierno del partido nacionalista vasco

reivindicaciones usted tiene una agenda vasca y presume de ir a madrid a negociar cosas una agenda vasca en la que solo hay trenes de alta velocidad

empresas parafraseando aquel cuyos dueños no viven en desiertos muy lejanos pero en su agenda vasca no está por ejemplo la derogación de la reforma laboral que es una de las causas del deterioro de las relaciones laborales en este país el crl ha constatado que los últimos años ha habido un aumento de la negociación en los convenios y que fruto de ese aumento ha venido una cierta

que esa recuperación ha venido de la mano de un incremento sustancial del número de huelgas no es este el gobierno

sino los trabajadores mediante la organización y la lucha eskerrik asko casanova jauna

parte hartzean eta inklusioan sakontzeko en el conjunto de mi intervención señor casanova

ecuánime en relación a esta cuestión y reitero esa ecuanimidad neutralidad que usted dice señor casanova ser ecuánime no significa ser acrítico no significa ser acrítico le voy a poner dos ejemplos distintos

se puede ser crítico con el uso de la violencia en un conflicto laboral se puede ser crítico con la reforma laboral y no sea usted porque le puedo demostrar además cuál es la postura que consejeros del partido nacionalista vasco entonces diputados en el congreso de los diputados

tuvimos como oposición ante la reforma laboral se puede ser crítico

somos críticos y espero que también usted lo sea en ambos casos y manifiesto mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras también con los empresarios de metal smelting metal performances drugstone oñate

espero que usted también lo sea en ambos casos y esto no significa posicionarse en favor de la representación empresarial

constatar que ha habido propuestas continuadas por una parte como constatar que ha habido una única propuesta por la otra no es posicionarse sobre quién tiene la razón es reconocer una

de los sectores fundamentales de la economía de euskadi están inmersos en un proceso de negociación y lógicamente con él de movilización para conseguir actualizar un convenio colectivo que lleva congelado demasiados demasiados los pasados meses de mayo y junio realizaron varias huelgas y varias jornadas de movilizaciones que fueron masivamente respaldadas por los trabajadores del sector

la propia policía municipal del ayuntamiento de bilbao

en bilbao recientemente en septiembre a final de septiembre principio de octubre como usted sabe los sindicatos convocaron

de huelga cinco jornadas de huelga que fueron también respaldadas masivamente por los trabajadores del sector en defensa de sus reivindicaciones y que tuvieron también un importante apoyo social en nuestra opinión en mitad de estas huelgas usted arrancó con unas impresentables declaraciones

que la patronal ya había hecho todo lo que podía hacer y acusaba a los sindicatos de no tener voluntad de diálogo en mitad de unas negociaciones cuando los sindicatos tienen planteadas unas reivindicaciones decir que la patronal ya ha hecho todo lo que puede hacer es decirles a los sindicatos que tienen que retirar sus demandas

no son legítimas algunas de estas demandas están destinadas a garantizar la seguridad en el trabajo están destinadas a actualizar sus salarios

unos salarios dignos después de años de congelación por lo tanto mi pregunta es

a los trabajadores y a sus representantes que tienen que renunciar a sus reivindicaciones en mitad de una negociación y un conflicto abierto eskerrik asko

escuche la transcripción de mi grabación que estará disponible supongo por los organizadores del acto en aquel día en todo caso y respondiendo a su pregunta

y a unos salarios dignos de hecho lograr más y mejor empleo es el objetivo prioritario de nuestro gobierno y creo que al decir más y mejor empleo

con la prioridad del país y la cuestión no es el objetivo señor hernández es acertar con el método más adecuado para alcanzar los objetivos que se desean y reitero tres planteamientos que podemos compartir desde el puesto de vista del método primero

inclusiva y participativa segundo diálogo con auténtica voluntad de acuerdo y tercero modificación de la reforma laboral modificación de la reforma laboral

la estructura de la negociación colectiva y de los convenios colectivos no se aprobaron y el partido nacionalista vasco votó en contra de la reforma laboral hemos seguido de cerca la situación del metal desde el día diez de mayo diez de mayo conozco el calendario de movilizaciones

de reuniones conozco las entrevistas publicadas a secretarios generales y representantes sindicales los llamamientos a tener un otoño caliente y a ser más contundentes que en las movilizaciones de mayo

en doce ámbitos conozco y constato que desde la primera reunión del diecisiete de mayo a la última de veinticinco de septiembre los sindicatos han mantenido la misma tabla reivindicativa desde el primer día

ha presentado nueve propuestas diferentes constato una realidad se ha avanzado y se ha avanzado en lo que es el proceso negociador desde el diecisiete de mayo hasta el veinticinco de septiembre señor hernández lo conozco perfectamente de lo que estoy hablando se ha avanzado y las posiciones se han acercado las negociaciones han seguido esta semana y espero espero que la solución esté

y precisamente por eso nos parece impresentable que en mitad de unas negociaciones y de unas movilizaciones usted haga este tipo de declaraciones de sus declaraciones yo he dicho dos cosas dos cosas que están dichas por usted usted taxativamente que la patronal ya había hecho lo que podía hacer y eso para nosotros es un mensaje muy claro es un mensaje a los sindicatos de que sus reivindicaciones ya no tienen cabida porque si la contraparte ya no se puede mover y esa es la opinión del gobierno en boca del lehendakari

cómo se puede aspirar a llevar a cabo sus reivindicaciones sus declaraciones señor urkullu le sitúan a usted en algo que nosotros le hemos dicho muchas veces que nos parece que este gobierno se sitúa siempre del lado de la patronal y contra los trabajadores nos parece que estas declaraciones son una muestra más de esto que nosotros venimos diciendo si estas declaraciones las hubiera hecho la patronal no nos hubieran llamado la atención si estas declaraciones las hubiera hecho algún partido político

criticado desde nuestra coalición pero allá cada partido dónde quiera situarse en la lucha de clases

aquí pero lo que nos parece impresentable es que sea el lehendakari el que se posicione de esta manera en un conflicto abierto porque con sus declaraciones al decir que la patronal ya ha hecho todo lo posible

que tienen que agachar la cabeza a los sindicatos y que tienen que aceptar lo que hasta la fecha haya propuesto la patronal yo no me meto en las propuestas de los sindicatos y en las de la patronal pero cuando se dice que patronal ya ha hecho todo lo posible se les está diciendo a los sindicatos

que por suerte los sindicatos no van a agachar la cabeza ni ante la patronal ni ante este tipo de declaraciones impresentables eskerrik asko hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

actitud impresentable y actitud irresponsable señor hernández es trasladar a la ciudadanía a la opinión público algo que yo no dije

es que diálogo con voluntad de acuerdo se ha hecho por parte de la patronal y he demostrado cuáles son los ámbitos de reivindicación en una propuesta cerrada por la plataforma única desde el diez de mayo

y eso no es más que constatar lo que es el proceso de diálogo en su caso negociación con voluntad de acuerdo

sobre las convocatorias de huelga y las propuestas realizadas por la federación del metal constatar esta realidad no es posicionarse sobre quién tiene la razón y yo no lo he hecho y no lo voy a hacer

porque lo único seguro es que perjudica a la empresa y por lo tanto a todas las personas que la integran entiendo que todo el mundo es consciente de las dificultades añadidas que afrontamos en momentos de desaceleración económica

entiendo que si hay unas propuestas presentadas y unas posturas no tan alejadas el acuerdo tiene que ser posible y abogo por concentrar todo el esfuerzo en el diálogo y en la negociación con voluntad de acuerdo

y herramientas para facilitarlo el gobierno vasco va a seguir

un cauce de solución acordada eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

presidenta señorías señora consejera de turismo comercio y consumo

la actualización de la ley de estatuto de las personas consumidoras y usuarias del país vasco una ley que tiene ya su inicio en el año dos mil tres

en estos dieciséis años el mundo del consumo ha sido alterado de una forma sustancial en estos momentos se consume de manera

nuevas formas de consumo también los sistemas de distribución son diferentes a los que había entonces los impactos de la

sustancialmente y todo esto exige una readaptación a los nuevos tiempos hablar del consumo es hablar de la producción es hablar de la sostenibilidad es hablar de la extracción es hablar de los desechos es decir es hablar de una política muy trasversal quizás sin hacer

por ejemplo nuestra propia crisis económica la crisis que estamos padeciendo aquí y que es una crisis internacional de la que todavía llevamos muchas secuelas

a un consumo del crédito y a una oferta del crédito que era excesiva que no tenía ningún apoyo en la economía real y con la que se especuló y luego además

pagándolos entre todos por tanto como digo con este ejemplo la política de consumo es una política trasversal y es una política que afecta de lleno directamente

a través del consumo se mide la igualdad o desigualdad que hay entre los ciudadanos a través del consumo se ve cómo hay nichos de personas

hay una vulnerabilidad porque es fácil vender productos sobre los cuales luego no hay un seguimiento no hay un resultado como el que se esperaba o como el que se promocionaba en la información pero además el consumo también

la capacidad que tiene nuestro propio planeta para poder abastecer esas tendencias de consumo que se están generando en una parte del mundo de una forma además multiplicadora mientras otra parte del mundo que quiere acceder a ella no

el consumo estamos ante una política que digamos

también sobre una ideología y para la cual es necesaria la intervención pública

de invitar a la ciudadanía a que el consumo sea responsable a que el consumidor esté informado a que los que son vulnerables puedan estar protegidos

de mediación cuando hay un consumo abusivo

métodos de sanción que permitan resarcir esos agravios que se producen entre quienes venden los productos y quienes los reciben o entre quienes venden los servicios

hay un proyecto ambicioso de su consejería hay un proyecto que pretende adaptarlo y modernizarlo de una forma sustancial darle un gran protagonismo a la protección a los consumidores y usuarios y esto que está en fase de anteproyecto de ley queremos que hoy tenga una expresión en este parlamento para que luego pueda tener continuidad en el resto de la tramitación por lo tanto le invito a que nos explique estas novedades muchas gracias

gracias presidenta egun on denoi señor prieto efectivamente es el momento de una nueva ley

las nuevas formas de consumo y el incremento de las nuevas tecnologías para efectuar las contrataciones exige entre otros factores una adaptación de la normativa vasca en materia de consumo

anteproyecto y que podré desarrollar en la comparecencia en comisión solicitada a petición propia son las siguientes

se incrementa la protección contra los abusos contractuales mediante la difusión de las cláusulas y prácticas empresariales abusivas una novedad relevante también a nivel autonómico es la posibilidad que la ley otorgará a kontsumobide para fijar

indemnizaciones a las personas consumidoras por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción sin duda esto supondrá una mejora de la protección de las personas consumidoras

se apuesta por el impulso de los códigos de buenas prácticas empresariales posibilitando la participación del instituto vasco de consumo en la elaboración de los mismos

hemos impulsado los sistemas alternativos de resolución de conflicto en la nueva ley se pautará en el sector público y en la contratación pública la adhesión al sistema arbitral de consumo y se valorará como mérito en la concesión de ayudas y subvenciones en los contratos de servicios de interés general como suministro de agua electricidad

antes de interrumpir la prestación y obligará a las empresas de servicios

afluencia de personas o condiciones meteorológicas se busca con esta medida que la persona usuaria tenga conocimiento de las condiciones del servicio para elegir con criterio

y por último y no menos importante la ley dotará de más y mejores herramientas a los servicios de inspección su tarea sea más eficaz y ágil el personal inspector podrá no identificarse cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación además podrá realizar compras de prueba bajo identidad encubierta para comprobar que los productos se ajustan

en definitiva una nueva ley que tiene como referente el objetivo doce de la agenda de las naciones unidas dos mil treinta producción y consumos responsables

impulsando cambios de actitudes y busca que las personas consumidoras actúen de forma reflexiva a la hora de comprar y optar por opciones sostenibles

el instituto vasco de consumo con su nuevo plan estratégico focaliza en la mayor proyección pública de sus políticas y el refuerzo del empoderamiento de la persona consumidora además se han reforzado las campañas de inspección y formación incluyendo por primera vez el trilingüismo

y se ha aprobado la carta de servicios de kontsumobide que recoge entre otros compromisos con la ciudadanía el responder las consultas en un plazo de dos días y las reclamaciones en un plazo
de diez completando la tramitación de las mismas en cuarenta y cinco días muchísimas gracias eskerrik asko eskerrik asko

se encomendó un imposible a una comisión de expertos designados por los grupos parlamentarios

traducir en un texto articulado conforme a la legalidad las bases que ustedes su partido pnv y eh bildu habían acordado para la elaboración de un nuevo estatus para el país vasco

cumple cuarenta años este mes el estatuto de gernika y ya lo ven viejo lo ven superado

y creen que no es un marco de convivencia que pueda servir a los vascos durante más tiempo o buscan una cosa que no sea un marco de convivencia porque el estatuto de gernika ha demostrado que sí que lo es

y designamos nuestro experto en esa comisión pensando en advertir de legalidad y usted nos dijo que confiáramos en dos cosas uno que esos expertos iban a ensanchar un consenso que había sido imposible en la propia ponencia en donde estuvieron representados quienes ejercen

y que además esa comisión iba a arreglar el dislate de las bases y que lo iba a ajustar a la constitución y al derecho

que yo estoy inquieto con lo que está pasando ahí que ustedes a través de las propuestas que hace su representante en esa comisión están

una propuesta que desborda la legalidad que no encaja en la constitución que quiere configurar una especie de país vasco semi independiente

pero es financiada por el resto de los españoles es un imposible absoluto y que además quiebra la soberanía porque plantean ustedes abiertamente el reconocimiento del ejercicio del derecho de autodeterminación pactado dicen con quien no puede disponer de

y por tanto todo esto recuerda mucho a un camino que ya recorrimos antes

de división social de conflicto de empobrecimiento de incertidumbre económica recuerda mucho ese camino

y me parece también que jugar con fuego tiene consecuencias no solamente las que hemos visto cuando se llega a un conflicto de imposible solución

y se alimenta a quienes todavía aquí no han renunciado a justificar años de odio de violencia de utilización del terror contra el adversario político y por tanto todo eso es jugar con fuego en la sociedad vasca y volver a dividirla y yo le pido a usted se lo he pedido varias veces pero se lo pido encarecidamente que frene y que ponga fin a esos trabajos y que renuncie a que en esta cámara pueda tomar cuerpo esa defensa del derecho de autodeterminación que ustedes plantean porque no tiene ninguna salida lleva inevitablemente a una colisión

y que renuncien a esa visión que parece tener permanentemente el pnv

porque este es un país plural y su propuesta rompe quiebra la pluralidad y la posibilidad

porque este mes de octubre o quizá a lo largo de otoño usted anunció en esta cámara que se iba a plantear un texto articulado le pido que renuncie a esa idea que vuelva a los márgenes de la constitución

aunque no sé si con el diez de noviembre terminará lo que estamos viviendo

no ha encargado ni al gobierno ni al lehendakari la redacción del nuevo estatuto político ustedes han decidido que sean cinco personas expertas propuestas por los grupos quienes elaboren

le contesto como lehendakari por mi parte he expresado respeto a esta opción y agradecimiento por el trabajo que se está realizando y me consta que está dando frutos y son más los acuerdos que los desacuerdos en eso que usted ha denominado imposible nunca

señor alonso he defendido y he respaldado una consulta legal y pactada que nos permita decidir el futuro político de euskadi ahora bien en este momento como lehendakari voy a respetar el acuerdo que se adopte en el seno de este parlamento y haré todo lo que esté en mi mano para favorecer el acuerdo

yo no sé usted pero a mí la labor que está desarrollando el grupo de expertos me merece insisto todo el respeto y no voy a ser yo quien desde fuera

junto a la actualización del catálogo de competencias considero fundamental

y esto es más que la expresión de una voluntad supone la aprobación de mecanismos legales que impidan a las partes modificar unilateralmente los acuerdos alcanzados ahora desde la extensión del acuerdo pacto tenemos la oportunidad

y actualizar los derechos que como pueblo nos han correspondido señor alonso

el futuro político de euskadi y la relación con el estado le invito a que lea la disposición adicional única del estatuto una y otra y otra vez así como el artículo uno del estatuto de autonomía esta relación ha sido posible o decidir el futuro político de una relación ha sido posible en otros ámbitos en canadá quebec o en el reino unido escocia

a una consulta legal y pactada señor alonso cuál es el problema el pacto bilateral con garantías no es algo nuevo lo hemos logrado con el concierto económico hemos demostrado las dos partes estado y euskadi que el modelo funciona

adaptarlo a la realidad europea reforzar la construcción institucional de euskadi y asentar el espíritu de pacto y bilateralidad con garantías

el estatuto de autonomía tan viejo como la constitución española que sí ha sido reformada a conveniencia aukera berri bat dugu ez dut ulertzen

desigualdades entre los españoles eta gero esaten du que hace que los estudiantes no tengan las mismas oportunidades

del estado que regulan el sistema de becas tienen carácter básico e impiden a la comunidad autónoma de euskadi establecer otro tipo de requisitos para ser beneficiarios

con cargo a los presupuestos de esta comunidad autónoma no con cargo al estado por lógica la legislación básica del estado en esta materia solo debiera operar respecto del sistema de ayudas y becas cuando se financian con cargo

mediante los recursos propios el tribunal supremo entiende por el contrario otra cosa y tenemos que aplicar los criterios fijados por la normativa del estado sin poder establecer criterios diferentes

de actividad administrativa que es la actividad de fomento

sin considerar las competencias sobre las que se ejerce es una forma de vaciar de competencias en este caso el estatuto de gernika muy claramente la competencia en materia de educación

el real decreto de traspaso de la competencia de educación también lo reconoce así

en el núcleo esencial de la competencia desde las condiciones para garantizar a todas las personas el acceso a la educación en condiciones de igualdad ha sido completamente ha ido absolutamente en contra y esas condiciones de igualdad a través de las becas a las personas que las necesiten ahora ya las decide el gobierno central y no el gobierno vasco me parece algo muy preocupante los criterios para otorgar becas con cargo a los recursos económicos de la cav se deben establecer aquí y no en el estado lo que se ha de garantizar yo creo es la igualdad en el acceso

eta hori uste dut ez dela onargarria la situación actual solo se puede calificar como un estado de excepción competencial lo he dicho en alguna otra ocasión

totalmente diluido y no es solo que el régimen autonómico se haya convertido en un sistema de gestión de decisiones ajenas sino que además con esta sentencia del supremo

y en qué hemos de gastarnos nuestros recursos es nuestro dinero es el dinero de cada una de las ciudadanas y ciudadanos

y el giro que en este ámbito se ha producido en la jurisprudencia del tribunal supremo creo que es muy grave y que nos coloca ante una realidad a la que hemos de hacer

las competencias que de acuerdo con el estatuto de gernika son plenas en realidad no lo son en la materia educativa que es concebida por el estatuto de gernika como una anclada

históricos se ha convertido en una materia competencial limitada a la ejecución ya no hay capacidad de decidir tan siquiera cómo y qué colectivos son beneficiarios de nuestras becas

la respuesta es mantener la firmeza y creo que acatar una sentencia es compatible con trabajar con tenacidad y creatividad también desde la unidad para mantener en estándar de calidad de los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía vasca en el ámbito de nuestras competencias

muchas veces se valora lo que se tiene cuando se pierde o se puede perder probablemente hasta ahora pocas personas valoraban en su justa medida lo que el sistema

ahora sin embargo parece que nos damos cuenta de ello la defensa de nuestro autogobierno reconocido necesita como primer paso que su valor y potencial deje de ser desdeñado o despreciado no es algo que ha caído del cielo tampoco algo que deba considerarse seguro y garantizado

invito a su grupo a dar este paso a dejar atrás el pasado a dejar atrás el pasado y tantas actitudes de desdén de desprecio

invito a su grupo a su defensa en el presente y a su proyección de futuro el logro de cualquier conquista necesita que se pongan los pies en el suelo partir de una base sólida aquí esa base es el autogobierno el autogobierno reconocido es la base y el cimiento el autogobierno singular es la columna vertebral del futuro estatus por el que usted me interpela

mirar al futuro es ser consciente de la situación del mundo global analizar la coyuntura europea la situación política española y comprender nuestra propia realidad sociopolítica y subrayo dos criterios

del nuevo estatuto en primer lugar el proyecto de futuro debe orientarse

nuestro autogobierno singular y en segundo lugar necesitamos desarrollar un itinerario viable sin callejones sin salida y el modo de hacerlo es la búsqueda incansable de acuerdos suficientes en todas las direcciones dentro de euskadi desde euskadi con el estado y en el ámbito de la construcción europea

nos pasamos la vida de alguna manera cerrando las vías de agua que nos abre el estado en la embarcación que

para que gastemos toda nuestra energía precisamente en cerrar las vías

nueva que seamos capaces de tener una embarcación en la que no nos hagan vías de agua y tengamos

con garantías con el estado español no le estoy diciendo nada muy diferente a lo que ha dicho usted pero usted me dice que bueno que tiene que ser un itinerario viable claro es que yo también quiero un itinerario viable o qué se piensa que quiero darme de morrazos

pero cuando usted me dice que tenemos que hacerlo con acuerdos

que no veten lo que la mayoría de este parlamento ha decidido y sobre todo quiero

a la ciudadanía porque con algunos acuerdos podremos hacer adelante y con otros acuerdos haremos atrás no tendremos posibilidades para dar respuesta a la ciudadanía y creo que desde luego en este ámbito y en otros muchos pues el estado español a ser gestores de lo que él en un momento dado decide

en ese sentido sea muy halagüeño creo que desde luego tenemos mayorías suficientes para trabajar otras posibilidades que como usted dice

civilizadas no tengo ninguna gana de que las cosas sean de otra manera pero es el estado el que

reitero que la apuesta estratégica del gobierno vasco estos cuarenta años ha sido el diálogo la negociación y el acuerdo y es el ejemplo del autogobierno progresivo

y creo que es necesario reconocer que es mucho lo que se ha conseguido y lo que se ha construido y que ha sido posible gracias a una estrategia basada en el realismo y la modulación

hablo de lo construido de lo real y estoy convencido de que en los próximos años esta estrategia seguirá dando frutos a pesar de que las coyunturas puedan ser

los datos de pobreza y desigualdades sociales del año dos mil dieciocho datos que curiosamente llegaron también cuando habían terminado las contiendas electorales no en las fechas comprometidas

que concluyen claramente que en dos mil dieciocho hay cada vez más personas que viven mal y lo hacen en todo caso insisto peor que hace dos años

dos euskadis dos velocidades velocidades que van imprimiendo cada vez una mayor brecha entre los barrios los pueblos los territorios y sobre todo

y no lo digo yo lo dice el departamento de empleo y políticas sociales

gastos que según definen los indicadores les permitan mantener

un treinta y siete coma cuatro más que el año dos mil ocho año de inicio de la crisis de cada diez personas hay dos que no pueden pagar un gasto imprevisto como que se te rompa un electrodoméstico en casa un cincuenta y cinco por ciento más que en el año dos mil ocho hay también más de ciento setenta y dos mil personas en situación o riesgo de pobreza

esto supone que a ocho de cada diez personas en este país les han cortado algún suministro o no pueden permitirse comer carne o pescado durante la semana

esto es un cuarenta y seis por ciento más que en el año dos mil ocho en los mismos años que las cifras de precariedad y desigualdad crecen el pib también ha crecido

pero parece ser que solo creció para algunas personas por ejemplo para las muy ricas que en este país en estos años han aumentado tanto su renta como su riqueza patrimonial mientras que las más vulnerables estaban y siguen peor a pesar de los grandes números barne produktu gordina gutxi batzuentzat bakarrik hazten

beraien errentak handitu dituzte hay ocho vascos entre las cien mayores fortunas del estado español ocho hombres que concentran más de cuatro mil ochocientos millónes de euros de la mano

y mientras el empleo de la gran mayoría social de este país cada vez más precario

pero lo hace fundamentalmente sobre los hombros de las personas que se han incorporado a trabajar al sector servicios un sector medio es un veinte por ciento menor que el del sector industrial un sector generalmente

en estos mismos años el salario medio prácticamente no se ha movido mientras la inflación como decía antes ha subido un ocho coma siete por ciento esto significa menor capacidad adquisitiva para los bolsillos de la ciudadanía porque los mismos cien euros de hace dos años hoy valen menos

veintiséis eran temporales once puntos por encima de la media de la unión europea y solo superada por el estado español y por montenegro además señor lehendakari en euskadi pasa algo curioso porque esa temporalidad es aún más alta en el sector público que en el privado

entre las personas que tienen contratos indefinidos y contratos temporales también atravesado por una brecha de género que nos dice que son a tiempo parcial más del cincuenta y tres por ciento de las nuevas contrataciones en las mujeres

de manera involuntaria soldata arrakala lan

en muchos ámbitos sigo euskadi en comparación con otros diez países de la unión europea incluido el estado queda a la cola en inversión en prestaciones sociales por hijas o hijos y por encima solamente de españa y estonia en prestaciones por vivienda euskadi en lo que va de año ha acumulado un aumento del tres por ciento en los precios de la vivienda

viviendas donde se configuran nuevos hogares que han aumentado en este periodo

hogares de personas jóvenes y de personas solas generalmente mujeres con hijas e hijos a su cargo

vemos también cómo ha empeorado la calidad de vida de las mujeres mayores que se ven cada vez en peor situación de hecho el número de mujeres solas de más de sesenta y cinco años en situación de pobreza o ausencia de bienestar

dos años y vemos también como es evidente que en euskadi tener hijas o hijos te hace

qué le dice su gobierno a las familias que tienen que tener una actitud positiva hacia la maternidad y la paternidad

es por ello que no entendemos qué están haciendo las instituciones de este país

un sistema de servicios sociales permanentemente en pañales se reconoce un derecho a la ciudadanía pero no se ponen ni los medios ni las leyes para poder ejercerlo un sistema que el propio gobierno afirma que no van a desarrollar

por otro lado un sistema de garantía de ingresos que con los datos en la mano demuestra

un sistema en debate en el que los partidos que sustentan al gobierno ponen en la mesa una reforma orientada a recortar

la pobreza y a las personas que se agarran a los mecanismos de protección públicos para poder vivir un sistema de vivienda ausente con un consejero que no termina

a una superviviente de violencias machistas con dos menores a cargo y un sistema de protección social y económica que ha tocado techo porque en él más de sesenta mil personas a pesar de estarlo usando no salen de la pobreza

no acceden a ningún sistema de protección social tenemos también una juventud que no puede emanciparse o lo hace extremadamente tarde y en condiciones de precariedad muy altas unas familias

que a sus deseos o anhelos y desde luego más que a las instituciones públicas que no paran de hacer anuncios

no ayudan suficientemente y ante una nueva crisis con unos datos de precariedad pobreza y desigualdad peores que en el año dos mil ocho nuevos retos que no pueden afrontarse con las recetas de siempre le oímos hablar señor lehendakari de brecha salarial de cambio climático de brecha territorial

y revertir los datos que su propio informe ha sacado a la luz egun bai zure gobernuak bai zure

y los datos son claros las familias están peor que hace diez años para afrontar una nueva crisis más familias endeudadas que no pueden pagar a tiempo sus facturas más familias con menos o ningún ahorro que hace diez años porque hoy ahorrar es el privilegio

y en definitiva más familias que penden de un hilo para no caer en la pobreza si no hay un escudo que proteja a la ciudadanía del impacto de lo que viene señor lehendakari mucha gente lo va a pasar mal en euskadi y es nuestra responsabilidad como oposición andar y hacer andar a su gobierno para que tome las medidas que sean necesarias

señora guanche tengo que confesarle que para mí es un placer debatir con usted aunque a veces la verdad después de lo que tengo que oír me cuesta no entrar a cuestiones

ni ciertas y es que en realidad compartimos las mismas preocupaciones usted y yo ambas anhelamos una euskadi cada día más igualitaria

de los que pueden parecer en un momento pero creo que su diagnóstico no es certero ni verdadero

en políticas sociales solo le pido que usted asuma un poco más la complejidad de nuestra sociedad la dinámica social de euskadi no es tan simplista como usted la presenta

por mucho catastrofismo que nos pinten usted y otros a golpe de rueda de prensa o también en estas intervenciones que realizan en el parlamento

tengo dudas de si vivimos realmente en el mismo país le niego la mayor señora guanche no se ha producido ningún empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca la interpretación de los resultados del módulo

de necesidades sociales dos mil dieciocho es una herramienta extensa compleja y completa que fue presentada de la misma forma que las veces anteriores ni más ni menos esta encuesta tiene ya una trayectoria de décadas que ayuda a reconocer tendencias y planificar medidas que sirvan para paliar las nuevas necesidades

participó toda una mañana de presentación de la encuesta por parte del responsable del órgano estadístico de nuestro departamento además también se le ofreció la posibilidad de profundizar en el conocimiento de los datos y tendencia de esta encuesta para que los interpretara de una forma correcta le animo a conocer con detalle la comparativa de euskadi con las dinámicas que se conocen en el estado español

europa de los veintiocho o de la europa del euro pero también con respecto a los países con políticas sociales más igualitarias de europa como pueden ser suecia

como aseguro el equipo autor de esta encuesta cada indicador tiene su importancia pero el análisis de la tendencia de un solo indicador no sirve para nada

y este error muestral lleva a los estadísticos a ser prudentes en aquellas interpretaciones sobre datos que se mueven en muy pequeñas horquillas

que nunca voy a estar satisfecha mientras haya personas en euskadi por pocas que sean en riesgo de exclusión le aseguro que desde nuestro departamento

creemos que la mejor política social es el empleo y el principal objetivo de esta legislatura bajar la tasa de paro del diez por ciento ya es una realidad

la fotografía de nuestra sociedad reflejada por esta encuesta indica que la mayoría de los vascos y vascas disfrutan de un confortable bienestar completo o casi completo

que todos los índices de desigualdad comparados con otras sociedades tanto el índice gini como el arope que bajamos un ocho por ciento desde el dos mil catorce al dos mil dieciocho o el indicador eurostat o la encuesta de condiciones de vida del ine nos sitúan

somos reconocidos como la sociedad o una de las sociedades más cohesionadas de europa y esto no lo dice este gobierno lo dicen las autoridades europeas los niveles de pobreza de euskadi son menores que la media de europa de los veintiocho y que la media de europa del euro y eso es una realidad

usted sabe como yo que estos índices y muestras dinámicas son muy parecidas a los de los países con políticas sociales más avanzados como pueden ser holanda

que la encuesta refleja también en sus indicadores la emancipación de jóvenes que se han lanzado en estos últimos años a vivir independientes pero por qué ha sido eso porque tienen mayores oportunidades porque la economía está dando oportunidades a los jóvenes para que puedan emanciparse

y eso señora guanche es una buena noticia usted es consciente de que los dos últimos años han llegado a euskadi

que han engrosado los porcentajes de personas en riesgo de pobreza y son dos fenómenos

y que afectan directamente a los resultados de esta encuesta la propia reforma de la renta de garantía de ingresos trataba de hacer frente al riesgo de pobreza a la sociedad a familias con menores a su cargo

hace tiempo presentamos esas iniciativas que están en este momento debatiéndose en la comisión de políticas sociales y que si hubiesen sido aprobadas en su momento

incidido en que los riesgos de pobreza de los vascos y de las vascas fueran de

privación material arope se haya reducido en un cinco coma seis por ciento cambiando la tendencia de aumento observada durante los momentos de crisis

miramos hacia los países más desarrollados hoy nuestra sociedad es próspera eso no significa que haya personas que en euskadi lo estén pasando mal

permítame una broma en una cosa tan seria como es el tema que estamos abordando a pesar de que euskadi

no vivimos en el sur de europa en materia de políticas sociales ni en ninguna otra materia estamos en el norte de europa nuestra sociedad es inclusiva y solidaria

tenemos no lo ocultamos dificultades pero tenemos que ser realistas y estamos avanzando

situaciones que tenemos que corregir nos sentimos orgullosos de nuestras políticas sociales de lo que hemos construido entre todos y todas y vamos a seguir trabajando adelante para no dejar a nadie atrás y nos gustaría señora guanche contar con su colaboración y con el resto de la cámara para poder adelantarnos y hacer frente a estas necesidades

la conferencia territorial de servicios sociales en madrid en la que se trataron temas importares como podrían ser la dependencia el alzhéimer las situaciones de pobreza y en esa conferencia territorial algunas comunidades trasladaban sus problemas y sus inquietudes

se encontraban en situación de riesgo de pobreza o de pobreza es verdad que tenemos todavía en euskadi mucho que hacer pero yo sí que me gustaría señora guanche que a pesar de que siendo una realidad también pongamos en valor todo el trabajo que estamos haciendo porque

para muchas comunidades autónomas y para el gobierno de españa es un ejemplo a seguir y es un ejemplo en el que van a analizar nuestras políticas para poder mejorar su situación y a veces que te reconozcan

creo que tenemos que seguir insistiendo y avanzando porque
tenemos muchas cosas hechas y creo que tenemos muchas por hacer mila esker eskerrik asko artolazabal

eskerrik asko mahaiburu andrea madre mía lo que hay que oír para mí señora artolazabal sin duda es un placer debatir con usted y con cualquier miembro de esta cámara porque para eso

me apena tengo que decir no obstante que ante un planteamiento global que yo le he hecho al señor lehendakari no solo se ausente sino que me responda usted parcialmente porque le he hecho una interpelación que tocaba más aspectos que van más allá de su departamento y usted además no me ha respondido nada no es una visión simplista no pero tampoco es mi diagnóstico es el suyo es el suyo

a que usted diga que no se ha producido ningún empeoramiento porque yo le voy a coger

un incremento significativo de los umbrales en especial el relativo al acceso al bienestar una dinámica general negativa en los indicadores relacionados con la pobreza energética un cambio destacado y relacionado repunte alcista en los hogares y margen para afrontar gastos extraordinarios

sin embargo el deterioro de los indicadores de ausencia de bienestar extiende esta dimensión de la precariedad con niveles comparativamente altos

en contraste con la pobreza de ingresos se consolidan los bajos niveles de pobreza en la dimensión de acumulación este es positivo vamos un poco por aquí

un aumento en las personas que utilizan prendas de segunda mano por no poder permitirse las de primera mano

un aumento en la privación material un aumento en las familias que no cubren gastos un aumento en las que tienen bajos ingresos y un aumento en las que tienen ausencia de bienestar no venga usted aquí a mentirle a la ciudadanía señora artolazabal que eso está muy feo en cualquier caso

que está en peores condiciones que hace dos años objetivamente con base a su diagnóstico no al mío con base al suyo

no hablo solo del departamento de empleo y políticas sociales he interpelado al departamento de vivienda he interpelado al departamento de trabajo y esto lo he hecho preguntándole al lehendakari precisamente porque queremos dotar de esa visión general además le voy a decir señora artolazabal que está muy feo

de los hogares de personas migrantes en mayor precariedad porque eso hace flaco favor a la convivencia pero no seré yo quien saque ese debate porque creo que no procede

el ejemplo claro de esto es cuando su gobierno saca los datos y el titular se basa en la percepción de las personas yo le digo una cosa señora artolazabal escúcheme

le tiendo la mano para que abramos un proceso de diálogo sobre por qué en euskadi vive peor que hace dos años y sin embargo no se considera

por qué pasa eso por qué las personas no se quieren considerar personas pobres será a lo mejor por pátina de criminalización porque las personas entienden

yo desde luego apuesto por lo segundo pero le tiendo la mano para que abramos un proceso de diálogo nosotras le hemos preguntado qué van a hacer y usted no me ha respondido

nada nuestra colaboración encima de la mesa sí pero para recortar no para aplicar lo mismo de siempre tampoco señora artolazabal porque eso

yo no sé por qué invirtiendo tantos millónes de euros el número de personas incrementa año a año si los datos de pobreza como dice usted no son relevantes o no empeoran dígame usted por qué dicen que la gente vive objetivamente peor esto no va de invertir más no va de invertir al peso va de invertir mejor y eso pasa por tomar acciones valientes y políticas nuevas porque las que estamos implementando no están funcionando los sistemas de protección están tocando techo y eso es claro señora artolazabal lo dicen claramente sus propios datos es indispensable reducir la brecha salarial territorial y social de la euskadi de dos de los ideales que ustedes están contribuyendo a crear

pero en la dirección justo contraria a la que ustedes han propuesto desde los partidos que sustentan al gobierno es necesario invertir en vivienda pública

no puede acceder a ellos es importante abordar el reto demográfico con soluciones

se le quedan insuficientes en necesario apostar por las personas jóvenes para que puedan emprender los proyectos de vida que quieran tener

en euskadi para que se les ofrezca una oportunidad y no solo precariedad gure taldearen aburuz ezinbestekoa da ordezkatzen ditugun pertsonei segurtasuna eskaintzea

y que todos tenemos que marcharnos de aquí porque aquí no tenemos futuro ni los jóvenes ni los mayores ni ningún otro colectivo o sea que euskadi según usted está

quiero repetirle lo que le he subrayado en un principio compartimos las mismas preocupaciones usted conoce esta encuesta le ruego por favor que no la manipule siempre

usted sabe que la encuesta refleja la disminución de la pobreza en los indicadores de alimentación o que se reducen las personas afectadas por cortes de suministro y esto lo dice la encuesta detrás de la mejora de estos indicadores también hay iniciativas paliativas lanzadas en los últimos años y si estamos en esta situación

y también usted y desde luego me parece muy feo como me dice a mí que me acuse de decir y de hablar de criminalizar y de que no me puede permitir

a tener unas oportunidades que esta sociedad se las está dando señora guanche que somos una sociedad acogedora

qué sociedad o qué comunidad autónoma está en este momento

para poder hacer su vida en este país me quiere decir solo una comunidad autónoma es que no hay ninguna la única que

de que nosotros tenemos que criminalizar a las personas migrantes las justas señora guanche las justas

sí que es cierto que se deteriora el acceso a ropa nueva o al ocio eso sí que se lo reconozco esta encuesta es una encuesta que desde luego nosotros la utilizamos para poder ir mejorando todas las políticas para poder ir acertando en las iniciativas que tenemos que poner en marcha porque es una encuesta como le digo completa y compleja pero es una herramienta útil para diseñar nuestras políticas pero también refleja profundos cambios sociales en los hábitos ciudadanos aumentan las personas en hogares sin ahorros y crecen los bajos niveles patrimoniales de reserva

es una realidad pero para toda la ciudadanía no solamente de esta comunidad autónoma sino de todo

todos los países desarrollados sí crecen también los hogares sin capacidad para afrontar un gasto extraordinario pero descienden

el riesgo de endeudamiento y eso también es una buena noticia si en los años ochenta la pobreza se situaba en más de un dieciséis por ciento y en la década de los noventa estábamos en el nueve hoy se limita al seis por ciento y eso señora guanche son datos objetivos le pido que se quede con apenas tres conclusiones de la encuesta usted luego haga lo que quiera

la percepción subjetiva de la pobreza apenas alcanza el dos coma siete por ciento de la población y el porcentaje de renta del diez por ciento de la población más pobre con respecto al pib está en niveles porcentuales por encima de los de suecia

sabe que en esta encuesta también le damos mucha importancia al sistema vasco como es el de rgi como es el de la pcv como son el de las aes la encuesta

al que apenas solo un dos coma ocho por ciento de la población no accede casi el total de la población vasca está protegida por el sistema de protección de euskadi no es perfecto señora guanche y queremos mejorarlo y queremos también tener un sistema más eficaz y eficiente desde la solidaridad y la inclusión

ayudar a las personas que peor lo están pasando en esta sociedad y si usted quiere señora guanche tiene mi mano tendida para que podamos llegar a acuerdos lo sabe desde el principio

arrimen el hombre para poder conseguir este objetivo siempre hemos sido un pueblo solidario por tanto no le admito que me diga que yo voy a criminalizar a ningún colectivo y la política social

yo le animo a sumarse a esos acuerdos y es que además

en los futuros compromisos que tenemos si en la negociación de presupuestos del dos mil veinte usted cree que hay oportunidades de mejorar a estos colectivos
nuestra mano estará tendida para alcanzarlos eskerrik asko artolazabal anderea

usted me menciona tres tipos de medidas que hay que adoptar yo diría que antes de las medidas hay que hacer una reflexión sobre por dónde ha ido la política

de internacionalización de nuestro país en estos últimos años una cierta autocrítica porque usted ha mencionado

en ese aparecen seis países con prioridad uno de esos seis países estados unidos y china nos están dando la espalda entonces hemos tenido la oportunidad de actualizar nuestra estrategia de internacionalización y sin embargo estamos incidiendo en aquellos países que siendo prometedores y eso no lo podemos negar sin embargo nos están dando la espalda entonces de alguna manera tendríamos que hacer una reflexión

hacia dónde queremos ir y en concreto respecto a la alimentación tenemos el pega dos mil diecisiete dos mil veinte que uno de sus ejes es la internacionalización nuevamente

y además la única medida que yo le he visto igual tendrá más concreta es la de anunciar ayudas por valor de dos millónes de euros al sector vinícola y en las declaraciones que hacen me llama la atención que expresamente le voy a leer dijera usted han coincidido

la relevancia que tiene el mercado de estados unidos impide renunciar a las exportaciones a ese país no es cuestión de que queramos nosotros seguir exportando no

por lo tanto incidir en lo mismo también de alguna manera no sé hasta qué punto es realista y viable y además

a reforzar sus estrategias de promoción en estados unidos no veo el sentido a reforzar nuestras estrategias de promoción en un país que nos está diciendo que no nos quiere yo le invito a que reflexionemos en ese sentido y a que desarrollemos nuevas estrategias para desarrollar por un lado los mercados locales que asuman parte de esa producción

producir en ecológico producir en alto valor añadido para mercados

no se van a comportar como seguramente se comportará trump con nosotros

eskerrik asko presidente andrea señor becerra precisamente creo que con quien hay que hacer la reflexión es con el sector con quien conoce realmente cuál es su producto y dónde lo tiene que vender y si algo hemos

seguimos en estados unidos seguimos en china seguimos en esos países que realmente son un mercado potencial importante y ayer hablábamos de además potenciar el mercado local

diversificar mercados y buscar alianzas en otros sectores que nos permitan tratar de llevar estos productos a otros lugares pero desde luego una reflexión sin el sector no tiene ningún sentido y en este caso si hay unanimidad de que

vamos a trabajarlo y a trabajarlo de la mejor manera posible eskerrik asko eskerrik asko sailburu

sobre los ratios de personal no se aporta en las memorias que acompañan al expediente justificación alguna sobre este particular debido a ello no cabe sino reiterar lo ya mencionado al comienzo del presente informe

que permita analizar la razonabilidad de las concretas opciones que recoge el proyecto esta opinión la vierte una letrada de su propio departamento es decir

el cuidado de miles de dependientes y las condiciones laborales de miles de cuidadoras sin ningún fundamento técnico pero no solo eso

y cuidadoras sin tener en cuenta la experiencia y la opinión de diferentes instituciones y entidades las normas pioneras en nuestro ámbito geográfico inmediato como la de gipuzkoa

las recomendaciones internacionales las aportaciones realizadas por las trabajadoras las preocupaciones que son muchas de las familias y así

veinte años está recortando el tiempo de atención directa que tienen las trabajadores para cuidar a las personas mayores eta zergatik

ordu gutxiagokoa da bizkaian eta gipuzkoan es decir las personas con dependencia van a recibir doscientos horas menos de atención al año

de que el nuevo decreto garantiza literalmente un mayor bienestar para las personas mayores no ha cosechado usted más que desmentidos por todas partes la diputación de araba ha manifestado que no hay impacto alguno ya que los ratios de personal de los centros gestionados de manera directa son superiores a las que vienen

atendiendo al concierto de prestación de servicio de residencia foral del dos mil diecisiete

del nuevo decreto y la diputación foral de gipuzkoa también ha manifestado que los ratios de personal ya se encuentran implementados la cosecha de desmentidos también incluye a su propia viceconsejera

del nuevo decreto en las residencias de gestión privada no es la única voz de su gobierno que deja en entredicho las condiciones de cuidado de la nueva regulación en el contexto de las diferentes convocatorias de huelga en las residencias de las personas mayores de gipuzkoa la consejera san josé que en este momento no se

ha ido aprobando diversas órdenes para garantizar el mantenimiento esencial de los servicios a la comunidad

a esas condiciones el departamento de trabajo y justicia entiende que solo con ochenta y siete minutos de atención directa a dependientes severos y grandes dependientes ochenta y siete solo con ochenta y siete minutos

residentes en cambio la nueva regulación aprobada por el departamento de empleo y políticas sociales la sitúa en solo setenta y siete minutos diez minutos por debajo qué debemos concluir de esto está el departamento de trabajo y justicia

o está usted consejera artolazabal comprometiendo la salud de las personas residentes

nuestra solidaridad y apoyo a las trabajadoras de residencias en huelga porque sin condiciones laborales dignas no se pueden garantizar servicios públicos

a ellas y a todas las que durante los últimos años están luchando por mejorar nuestro sistema de cuidados les damos las gracias beraiek bai ari direla sistema publiko hobetzen beraiek

y permítame darle la bienvenida a esta tribuna parlamentaria ongi etorri

trayectoria institucional no tengo la menor duda de que vamos a debatir mucho y con intensidad sobre políticas sociales hoy nos toca una interpelación sobre el decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi este decreto supone un avance en la consolidación del sistema vasco de servicios sociales y seguimos dando pasos bien asentados desde la coordinación entra las instituciones la subsidiariedad y la colaboración con el tercer sector

en la planificación del sistema vasco de servicios sociales buscamos siempre avanzar desde el respeto a las necesidades y características de la red de atención en cada territorio

tratamos también siempre de respetar la autonomía de cada institución

mejorándolo de forma continua a partir de las realidades preexistentes en la elaboración de este decreto

para poder ir avanzando decenas de reuniones con muchas aportaciones y con grandes dosis de escucha

ambiciosas decisiones siempre en la búsqueda de consensos desde una realista base de un mínimo común denominador quiero dar las gracias en primer lugar a usted señor rodríguez y no lo hago con ironía de verdad se lo digo

este proceso de participación y de contraste que ha dado lugar a la aprobación de este decreto se inició ya en el año dos mil catorce

entonces usted era el responsable del área de

durante su mandato el equipo técnico de la diputación de gipuzkoa acudió a más de una decena de reuniones técnicas para ir avanzando en los mimbres de este decreto con posterioridad también con los mismos técnicos en la diputación

y quiero darle de verdad las gracias por la implicación

institucional de entonces en relación a los argumentos de su interpelación trataré de explicarle algunos aspectos de este decreto el decreto sí que mejora los ratios de atención directa a las personas de grado cero y uno de dependencia y en un veintitrés por ciento más en los grados dos y tres de dependencia

teniendo en cuenta de que cuando hacemos estas cuentas no se tiene en cuenta más que el personal

me gustaría también darle algunos detalles de este proceso multilateral participativo del que surge este decreto en este trabajo coordinado una de las primeras decisiones adoptadas fue la de realizar un decreto exclusivo de centros residenciales para personas mayores

medidas prioritarias iniciales que se tomó cuando se inició este trabajo se recopiló la normativa específica existente en materia de los tres territorios históricos para

creo recordar que también la normativa referente a gipuzkoa se remitió a nuestro departamento siendo usted diputado en la legislatura pasada y para la elaboración del primer borrador de este texto se realizaron más de diez reuniones del grupo de trabajo

sucesivas reuniones la mecánica de funcionamiento era la realización de propuestas previamente elaboradas en las distintas administraciones intervinientes

en las reuniones grupales en el año dos mil diecisiete ya en esta legislatura se dio a conocer al parlamento vasco la estructura y el contenido básico que tendría

que en febrero instaba al gobierno aportar un texto en el plazo de tres meses en junio del dos mil diecisiete se inició el trámite de consulta

se recibieron numerosas aportaciones el proyecto también se sometió al trámite de audiencia previsto en la normativa vigente enviando el proyecto a veintiséis colegios y entidades y se recibieron también múltiples alegaciones todo esto para que vea que sí que se hizo de forma participativa y que no nos lo inventamos en el gobierno

todas las aportaciones han sido analizadas y debatidas en esos grupos de trabajo y este decreto incluye alegaciones formuladas entre otros por zahartzaroa el colegio de trabajo

en definitiva por muchos agentes que tenían algo que decir en relación a este decreto

a la oficina de control económico y al consejo económico y social vasco

un informe preceptivo y ese borrador de decreto tuvo en aquel órgano veinte votos a favor uno solo en contra y dos abstenciones por tanto este decreto obtuvo una mayoría más que cualificada para seguir su tramitación

todas las aportaciones que todos los agentes y todos los sí agentes daba igual de la condición que fuera quisieron realizar

se presentó una memoria económica complementaria porque también era un requisito que teníamos que cumplir y toda la información relacionada con la tramitación se encuentra a disposición de todos ustedes y de toda la ciudadanía en la página web de este parlamento gainera esan behar da egoitza zentroen dekretua

importantísimos como son garantizar a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal necesaria eso era la prioridad del decreto en segundo asegurar que las personas usuarias mantengan sus relaciones y participación

y por último favorecer su sentimiento de seguridad este decreto impulsa la transición a un modelo de atención residencial más institucionalizado pasando de ese modelo institucionalizado a uno más comunitario y centrado en la persona y en sus capacidades asimismo el decreto define que el modelo de atención

individualizada donde la participación de la propia persona y su familia es fundamental y todo en coherencia con lo que dice la ley de servicios sociales el decreto este por tanto se ajusta también a los criterios de calidad establecidos en el marco europeo de voluntariado de calidad de los servicios sociales y en la aplicación de este enfoque comunitario señor rodríguez hemos ido avanzando en este decreto

pues le tengo que responder que lo vamos a hacer con ambición pero también con responsabilidad

y eso implica poder sostener presupuestariamente es decir garantizar lo que se compromete en las normas y el ahora sustituido decreto el que está ahora

ese del año mil novecientos noventa y ocho ya comenzaba señalando cuál era su finalidad y decía

superar las deficiencias observadas en el citado decreto doscientos dieciocho barra mil novecientos noventa fundamentalmente en lo que establecía requisitos de muy complicado

en este decreto hemos intentado y hemos hecho un ejercicio de mejora verificable respecto al decreto anterior
pero también de responsabilidad señor rodríguez eskerrik asko

cuando estábamos realizando las estimaciones del impacto real sobre el personal de su decreto

era no tiene estudios de dónde han sacado esta cifra pues es muy sencillo han hecho ustedes un modelo al final lo conseguimos descubrir han hecho ustedes un modelo que vamos a llamar modelo de acuerdo

coger la ratio para personal directa de las cuidadoras de acuerdo ha vuelto a viajes veinte años al futuro lo ha puesto en el nuevo decreto

y además el perfil de los dependientes y sus necesidades se han incrementado muchísimo

es que la atención que debía garantizar una residencia hace veinte años es menor que la que tendrá que garantizar a partir de la publicación del nuevo decreto

dice usted bueno yo he le dicho lo que opinan las tres diputaciones sobre el impacto real en la atención

si usted la cesará porque la ha llevado la contraria pero como usted pone en duda mi palabra pues vamos a leer una de las alegaciones recibidas que es la alegación recibida a su decreto la alegación presentado por lares que es la asociación vasca que gestiona lares euskadi me refiero la asociación que gestiona más de treinta centros y más de mil centros

las diferentes combinaciones de perfiles cero uno dos y tres podrían originar que incluso en el nuevo decreto supusiera menores necesidades de personal de auxiliares de

no se observa una evolución en la identificación de perfiles de atención han pasado prácticamente veinte años y siguen dividiéndose en dos grandes grupos equiparar grado cero y grado uno

empírico dice sobre su decreto su decreto es un absurdo empírico

en definitiva un borrador de decreto con mucha letra muchas exigencias procedente de normativas tipo iso

como la sensibilidad real de las ratios de personal a los perfiles de los residentes esto dice sobre su decreto mire

en mi primera intervención provienen de las residencias de gipuzkoa

treinta minutos más de atención diaria más de los que usted consejera

treinta minutos más aún y todo vemos que las personas usuarias sus familias las trabajadoras no tienen tiempo suficiente de cuidado tiempo suficiente de afectos mire no estamos hablando de un servicio público accesorio o de segunda

de cómo pasan sus últimos años de vida de cómo son atendidos cuidados considerados tratados desde que se levantan se les asea se les viste se les ducha se les sonríe se les pregunta qué tal se sienten o se les da de comer del tiempo que una cuidadora les dedica además

todas algún día usted yo nuestras madres nuestros padres

mire pasar por un departamento durante cuatro años y no pensar realmente en cómo hacerlo mejor a mí me parece una gran irresponsabilidad es no darse cuenta de la magnitud de lo que se está regulando

y no están pensando en hacerlo mejor de hecho están haciéndolo peor están regulando vidas peores

está regulando que las trabajadoras tengan menos tiempo para cuidar para atender y para tratar con dignidad este decreto no mejora empeora la atención de las residencias a los hechos me remito

y no incluye más servicios y no se van a dar más servicios sino menos

reflexione retire este decreto porque es un auténtico despropósito

lo dicen las propias entidades y va a provocar un daño irreparable a la dignidad de las personas con dependencia que pasan los últimos años de su vida en las residencias que están bajo su responsabilidad no se escude en

este decreto fija unos requisitos mínimos a cumplir pero a partir de estos ambiciosos mínimos las diputaciones pueden mejorar lo que estimen oportuno eso para que empecemos

lo que no hace este decreto es regular las condiciones laborales ni las negociaciones del convenio de las trabajadoras de las residencias y espero y confío

son muchos los aspectos de mejora que tiene este nuevo decreto con respecto a la norma precedentes

y viene usted y le intentamos explicar todas esas mejoras que parece que usted no las ha debido detectar

no solo mejora los ratios del decreto de mil novecientos noventa y ocho en los centros residenciales sino que además introduce otras mejoras relevantes relacionadas con la calidad de la atención

que retire el decreto porque las asociaciones no lo quieren pues en el consejo vasco de políticas sociales le he dicho anteriormente veinte votaron a favor

un apoyo mayoritario en ese consejo y creo que la retirada del decreto

como usted bien sabe el sistema vasco de servicios sociales está participado por los tres niveles de las administraciones públicas vascas y la competencia normativa del gobierno

interinstitucional y atendiendo a la trayectoria previa y a la realidad de cada territorio como lo hacíamos

avanzar porque las políticas sociales como usted bien sabe están divididas en diferentes ámbitos territoriales y sus competencias y ese también es un enfoque comunitario qué hemos hecho para garantizar el bienestar y la correcta atención a estas dieciocho mil pues subrayo el verbo garantizar

y le voy a enumerar rápidamente si me da tiempo una serie de iniciativas que creo yo que son de máximo calado y no quiero abrumarles pero este nuevo decreto

establece una estructura modular con un máximo de veinticinco plazas también habla de una atención personalizada

de una nueva concepción del principio de autodeterminación del enfoque de planificación centrada en la persona y además es que cuando se hacen las encuestas de los servicios

que prestamos las instituciones vascas a las personas residentes en las residencias qué todo es mejorable sin ninguna duda pero hombre lo que estamos haciendo desde las instituciones y desde las asociaciones que gestionan esas residencias

lo mismo que el trabajo de los profesionales que trabajan en ellas también el decreto mejora el porcentaje de habitaciones individuales los requisitos de las personas a la hora de hacer

el personal de atención indirecta como le he dicho anteriormente habla de los equipos multidisciplinares de las titulaciones idóneas de la atención sanitaria de la fisioterapia en fin

de un montón de iniciativas que desde luego creo que también son muy importantes para mejorar la calidad de los servicios que a las personas mayores se les está prestando en las residencias también hablábamos de las directrices en cuanto al riesgo y las sujeciones físicas el uso combinado de las estancias diurnas o temporales aprobar mejorar y en tercer lugar avanzar y todos estos aspectos son indudablemente avances respecto al decreto anterior

institucional que requiere comprometer normativamente a terceros cuando son ellos quienes asumen la gestión y la financiación del servicio regulado

espero que debatamos mucho pero creo que la actitud respecto a este decreto

exigente leal y facilitadora creo que también

que ha sido consensuado con las tres diputaciones con el consejo de políticas sociales de euskadi es un buen decreto que va

y que va a hacer que sean las condiciones mejores de las que tuvieron anteriormente mila esker eskerrik asko

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi pues otra vez señora

interpelaciones con esta van cinco pero es que las circunstancias y sobre todo el balance de su gestión al frente del departamento de empleo y políticas sociales y asuntos sociales pues lo merece no podía ser de otra forma que

de alguna forma ha abanderado muchas iniciativas en relación a las políticas

pues viendo lo visto y la inacción absoluta de este gobierno en esta materia

presentar nuevamente la quinta interpelación en la anterior hablábamos de si era posible prácticamente hace menos de un año

que el gobierno efectuara o realizara un giro en las políticas de familia de ayudas a la familia de conciliación de corresponsalidad

de que acabe la legislatura se puede hablar ya claramente de

en cuenta el cierto espectáculo que ustedes están que se está viendo en relación a alguna de sus medidas

poner en marcha que por cierto todavía no es una realidad guretzat

ekimen honetatik mozio bat egitea como le decía el balance es absolutamente negativo no han hecho nada y además lo

encima lo hacen mal mire le voy a hacer un recordatorio

en la excedencia voluntaria por paternidad pero

se ha demorado absolutamente la aprobación del marco que recoge las líneas de actuación en medidas concretas la estrategia vasca de inversión a las familias y la infancia se aprueba en enero de dos mil dieciocho

y usted es consejera desde el año dos mil dieciséis por lo tanto alguna responsabilidad en liderazgo

a asumir la evaluación de este plan también llega tarde porque llega en el año dos mil diecisiete

acaba su vigencia en el dos mil quince llega en el dos mil dieciocho

en la aprobación de los marcos que recogen las medidas concretas y que además ustedes tienen competencias específicas y concretas y algunas además de forma

es que luego se han demorado en la aprobación de los instrumentos necesarios para implantar es decir las herramientas concretas que tienen que recoger esas ayudas

correspondientes la única medida aprobada hasta la fecha señora consejera es el incremento de una dualidad de dos a tres años por el segundo hijo pero es que sabe

y llegó el año pasado en verano en el dos mil dieciocho y ya hombre con efecto retroactivo porque ya

hay que recordar que además se lo pasaron en blanco pero es que además para más a más ustedes tenían disponibilidad tenían dinero tenían dinero para gastar y han sido

de impulsar los decretos correspondientes y acelerar su tramitación las modificaciones para gastar el dinero que encima además se lo ha incrementado de forma significativa el partido popular a través de sus enmiendas mira si vemos la ejecución del presupuesto de dos mil diecisiete treinta coma siete millónes ustedes ejecutaron veinticinco coma siete millónes les sobró dinero en políticas de familia en la partida gorda de conciliación treinta y uno millónes

pero es que la historia se repite en el dos mil dieciocho porque me puede decir bueno pues el primer año de legislatura entre que me pongo no me pongo tal bueno usted es consejera es la máxima responsable le tengo que recordar

se ejecutan veinticuatro o sea ya no estamos hablando de dos o tres millónes menos de diez millónes menos si hablamos de las ayudas a la conciliación de treinta y tres millónes veintidós se ejecutan pero es que luego llega su medida

a bombo y platillo como es costumbre en su departamento anunciar las cosas a bombo y a platillo eso sí luego ya veremos cuándo se ponen en marcha porque las cosas de palacio van despacio parece ser el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho la anuncia aquí en esta tribuna a propósito del pleno monográfico

y de reto demográfico hace su propuesta estrella anuncio que tenemos que decir que después de año y medio después

porque han aprobado una ayuda por lo menos para unas semanas no tan ambiciosa como ustedes pensaban pero que también de paso les ha venido muy bien

sino que a la semana que da usted a conocer y publicita también a bombo y platillo

su borrador de decreto lo tienen que rectificar tienen que rectificar su contenido porque lo han hecho rematadamente

ustedes no sé qué visión tienen de país y de las personas

se han permitido el lujo de establecer unas condiciones adicionales para los trabajadores en el ámbito privado que no tienen los trabajadores en el sector público pese a las continuas advertencias

informes a los que ahora me voy a remitir discriminaciones que tienen que ver con establecer requisitos adicionales que hacen que esta medida sea absolutamente discriminatoria respecto a los trabajadores en el sector público

en el sector privado dieciocho semanas es que ustedes establecen requisitos

me voy a dedicar a ahora me voy a detener en ello

porque ha sido además objeto de recomendaciones específicas en algunos informes como en un informe propio de su propio departamento en el informe del ces en el informe de la cojua sencillamente señora consejera

les exigen que tengan que contratar una nueva persona a tiempo completo yo entiendo

una excedencia al progenitor no gestante remunerada voluntaria y que asume que va a pagar el sueldo y la cotización a la seguridad social no puede ser fácil porque obviamente no se trata de pagar unas vacaciones yo eso lo entiendo señora consejera

es que ustedes teniendo tanto tiempo desde que anuncian la medida que además que entiendo cuando ustedes anuncian aquí la medida el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho ustedes ya tenían pensada esta medida

visto lo visto pero es que ustedes han tenido año y medio es que ustedes tienen advertencias en informes concretos me voy a referir al informe del ces

de fecha diecinueve de julio de este año en el que se dice claramente que no se comparte la exclusión que pone este artículo en relación a los requisitos de las personas beneficiarias respecto a que la empleada de hogar ya que puede que está realizando en la unidad familiar

que tiene como objeto esta medida además esta limitación podría impactar negativamente en las condiciones laborales de la persona empleada de hogar lo mismo una advertencia del ces y ustedes en su último borrador de decreto es que ni lo modifican y lo modifican respecto a las empleadas de hogar

un cierto escándalo y un asunto un tanto lamentable

del gobierno vasco y de su departamento y usted como responsable mire yo solo le voy a decir porque tengo poco tiempo y seguiré en el segundo turno que ustedes desde luego

su gestión es pésima que desde luego el balance no podía ser peor y que encima para colmo se han visto frustradas las expectativas de miles

con la que estaba y con la que tenemos iba a hacer algo pero es que ustedes no han hecho nada de nada eskerrik asko garrido

eskerrik asko señora garrido volvemos a debatir como decía usted en esta tribuna sobre las políticas de apoyo a las familias es todo un clásico entre usted y yo

era una de las claves de la sociedad vasca un reto de presente y de futuro y me da la impresión que a pesar de que lo niegue usted es la más convencida partidaria de los planteamientos del lehendakari

nos permite que en este parlamento se otorgue una especial atención a las políticas de apoyo a las familias así que muchísimas gracias señora garrido

afirmación rotunda y es que el gobierno vasco está dando un apoyo decidido a las políticas de familia no puedo estar más en contra de sus afirmaciones

demostrando a lo largo de mi intervención si no es en esta primera parte será en la segunda para el desarrollo de numerosas medidas el gobierno ha previsto una inversión para el periodo dos mil dieciocho dos mil veintidós que asciende a mil setecientos sesenta y cuatro millónes de euros mil setecientos sesenta y cuatro hasta el dos mil veintidós de esa inversión

son directamente gestionados por el departamento de empleo y políticas sociales y en dos mil dieciocho todas las instituciones suscribimos un pacto vasco por las familias y por la infancia este acuerdo recogía acuerdos concretos y claros

este acuerdo fue aprobado por unanimidad en el consejo vasco de familia y por tanto en el año dos mil dieciocho y en este año dos mil diecinueve

de todas las iniciativas que claramente apoyan a las familias vascas que tenemos que hacer más por supuesto pero que hemos hecho también muchas también señora garrido así que no siga por favor anclada en su discurso cargado de nubarrones y totalmente alejada de la realidad porque no es verdad no compitamos usted y yo en algo que tenemos

nos queda un largo recorrido y hemos cumplido con todos los compromisos

el gobierno vasco subraya la importancia de las familias como núcleos de relación humana y de educación social afectiva y comunitaria y promovemos políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares

la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles intentamos superar dificultades económicas o laborales que puedan impedirlo y promovemos la progresiva eliminación o reducción de los obstáculos que dificultan poder iniciar un proyecto familiar y tener el número de hijas e hijos deseados me gustaría

en primer lugar el apoyo económico a las familias con hijos e hijas y prevención de la pobreza infantil hemos incluido en la reforma de la ley de garantía de ingresos y la inclusión social medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da a las unidades familiares con hijos e hijas a cargo eso usted lo conoce perfectamente

a apoyar estas reformas como herramienta para ayudar a las familias vascas vulnerables

proposición de ley contemplábamos una reducción de periodo mínimo

a dos años para las familias con hijos menores planteábamos una revisión de las actuales cuantías con un complemento por cada menor a cargo hasta los límites máximos que establezcamos

establecíamos igualmente otro complemento de esta reforma para personas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar

la ampliación de las ayudas por segundos hijos y segundas hijas en una tercera anualidad en cuanto a lo que tiene que ver con algo importante también para las familias

se introducen criterios de discriminación positiva para el acceso a programas de vivienda a familias con hijos e hijas en situación de especial necesidad

de la población juvenil a la vivienda en alquiler en el mercado privado mediante la prestación económica y dentro del programa gaztelagun

que se llevó adelante y este objetivo como usted bien sabe está en vigor para este curso académico

yo quiero reconocer en esta tribuna y subrayar que esta medida ha sido fruto del esfuerzo conjunto de los grupos parlamentarios y en su capacidad para llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía

en ese pleno monográfico y por último más y mejores ayudas por excedencia laboral

las ayudas existentes por excedencia laboral para garantizar la cobertura económica

como sabe esta va a ser una ayuda complementaria de ocho semanas adicionales a las actualmente establecidas por la seguridad social un importante y pionero esfuerzo que permitirá

remuneraremos con un cien por ciento de la base de cotización siempre durante el primer año de vida del bebé y siempre en periodo distinto al del cónyuge gestante

se producirá la modificación del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez para dar cobertura a estos supuestos esta tramitación del decreto se ha hecho por vía urgente para poder cumplir con esas expectativas

con el objetivo de beneficiar a las familias vascas para que puedan acogerse a estas ayudas porque tiene dos objetivos sobre todo estas ayudas el primero sería favorecer la corresponsabilidad en el cuidado de los padres o de los cónyuges no gestantes de los bebés

lugar y también muy importante trabajar por la igualdad entre los hombres y las mujeres

ha sido contrastado con agentes sociales y este decreto ha sido aprobado por unanimidad y sin votos en contra en el consejo vasco de familias en el que se nos ha reconocido el esfuerzo que este gobierno

innovadora y pionera y de verdad señora garrido nos ha costado técnicamente mucho el poder concretar y definir en qué consistían

y que nosotros desde las políticas sociales lo que hemos hecho ha sido complementar

los permisos o para igualar y conseguir esos objetivos de corresponsabilidad en el cuidado

y de igualdad y desde luego yo no le voy a admitir que diga que ha sido caótico nosotros desde luego no filtramos ese borrador ese borrador los medios de comunicación

un resumen de lo que allí aparecía pero todavía era un borrador y ese borrador estaba sujeto a diferentes informes y todavía

y necesario mejorarlo por tanto hasta que ese decreto no esté aprobado

son dos planos diferentes lo que tiene que ver con los funcionarios con lo que tiene que ver con los empleados privados de las empresas privadas y yo como consejera responsable de las políticas sociales y este gobierno sin tener competencia en materia de seguridad social

intentar complementar esos permisos que el estado ha subido a

las mismas condiciones que las madres para que puedan corresponsabilizarse en el cuidado de los bebés también hemos hecho otra serie de cosas señora garrido como usted bien sabe el proyecto kontzilia treinta empezamos con un pilotaje de tres estamos ya en treinta y vamos a ampliarla a todo euskadi durante el año dos mil diecinueve hemos hecho

paralelamente también vamos a trabajar en la difusión de estas experiencias vamos a reforzar los programas de parentalidad positiva y de mediación familiar y usted también conoce perfectamente

es porque no tenemos solicitudes que atender porque todas las que se solicitan se atienden el cien por ciento de los casos el problema es que no hay suficientes nacimientos

que tenemos destinada para esas cuestiones

que aparece en el plan como es el órgano de coordinación tributaria para que podamos analizar y gestionar

vamos a seguir trabajando en numerosas iniciativas en la segunda parte le concretaré todavía más iniciativas que hemos puesto en marcha para que vea que este gobierno funciona

diría que más bien no funciona mucho y funciona como funciona mire yo pensaba que la propuesta de modificación de la

porque es una proposición de ley pero usted aquí ha dicho incluimos incluimos por lo tanto está claro que era una propuesta de gobierno para eso podían haber presentado un proyecto de ley no es que era su compromiso presentar un proyecto de ley pero bueno ya vemos

elige la fórmula que eligió y así salió el texto que salió mire es que la interpelación va dirigida a usted va dirigida a usted con contenidos muy concretos de los compromisos que usted ha adquirido y usted lleva como consejera desde el año dos mil dieciséis y usted ha llegado tarde a probar los instrumentos

le he citado el único decreto en relación a las ayudas que ustedes

dos mil dieciocho el decreto por excedencia es por paternidad pues una auténtica chapuza señora consejera es que le tengo que decir que no nos lo venda más es que ya nos lo ha vendido nos lo ha vendido nos lo ha vendido muchas veces y es que nos lo anunció aquí el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

a día de hoy está sin aprobar y a día de hoy ustedes lo tienen que estar modificando porque ha sido una auténtica chapuza y lo han tenido que modificar a raíz de que han tenido varios titulares de periódicos y alguno de ellos de larga tirada en el país vasco y algún

no se dignan a modificar un decreto que era una chapuza y que venía mal y que tenían advertencias de sus propios informes internos señora consejera qué quiere que

que son frustrantes los argumentos que señalan la imposibilidad de aceptar determinadas enmiendas

una mayor gestión en el propio procedimiento de las ayudas qué quiere que le lea estas cosas que le han dicho órganos asesores del propio gobierno

de que los requisitos que se establecen para los beneficiarios en el sector privado son absolutamente discriminatorios respecto a los

qué quiere que le diga que esos informes de fecha de mayo de junio de julio y usted los está modificando esta semana y no en todos los aspectos porque solo ha modificado lo de las empleadas de hogar y también tienen advertencias en relación a las guarderías

advertencias en relación a otras cuestiones usted lo está modificando ahora lo está modificando ahora a raíz de que este tema salta a la opinión pública porque si no

menos mal tiene una semana tiene una semana porque dice que lo va a traer el veintidós por lo tanto señora consejera mire sus anuncios a bombo y platillo como le decía que nos ha vendido en reiteradas ocasiones a día de hoy nada de nada señora consejera nada de nada

sobre cuestiones que a día de hoy no se han cumplido por parte de los departamentos pues no yo misma sino nuestros portavoces responsables en cada una de las materias como ya hacemos normalmente dirigiremos las iniciativas correspondientes me dice usted

la crítica y usted tiene que reconocer que es su responsabilidad y que no lo podía haber hecho peor en esta materia claro nos dice que es que no tiene solicitantes

se hablaba de incrementar cuantías incrementar anualidades esta parlamentaria también le ha hecho propuestas para que usted modifique el criterio de renta estandarizada

el problema de la natalidad dígaselo a las familias vascas dígaselo a las familias vascas que algunas de ellas están recibiendo

dígales que les sobra dinero y que por su incapacidad

en el presupuesto para poder aumentar las ayudas a la conciliación y las ayudas por nacimiento por hijos dígales que es por su propia incapacidad y porque al final da la sensación de que no se creen y no tiene la voluntad política de ayudar a las familias

ahora también se han sacado de la chistera lo de elaborar una estrategia dos mil treinta

estrategia interinstitucional de cambio demográfico y rejuvenecimiento de la sociedad vasca

y ustedes votaron que no si nosotros propusimos un paco a nivel de toda la comunidad del país vasco entre el gobierno vasco entre las diputaciones forales
para poner en marcha una estrategia que abordara esta cuestión eskerrik asko garrido anderea

bueno señora garrido yo creo que usted tiene claro que el compromiso de este gobierno con las familias es claro usted sabe como yo que el éxito de estas políticas se sitúa en el largo plazo con paciencia y con estabilidad en las medidas

gobierno y por tanto yo podré explicar cuáles son las políticas de familia de todo el gobierno y en el plan de apoyo a las familias y la infancia nos

indicadores muy exigentes porque ustedes también lo conocieron sabíamos que su éxito

y bueno esto para que suceda no solamente lo vamos a impulsar desde las instituciones que sí que tenemos un papel muy importante y que lo tenemos que liderar y eso yo sí que estoy haciendo pero también tiene que ver con cambios sociales y culturales muy profundos con cambios de valores

las transformaciones a muy largo recorrido con las tendencias crecientes con decisiones personales con nuevos modelos de vida con diferentes prioridades vitales y todo eso afecta

al número y a la formación y a la configuración de los distintos modelos de familia que tenemos en euskadi y en los países desarrollados recientemente desde esta misma tribuna el lehendakari como usted bien decía subrayaba que el gasto público para las familias en euskadi se ha triplicado en los últimos años

como reto para los próximos años también el aspecto demográfico y también las políticas sociales y que la inversión en las familias y las instituciones vascas había pasado del cero coma veintidós por ciento del pib al cero coma setenta y uno en la actualidad

euskadi es la única comunidad de todo el estado que invierte más en conciliación y en ayudas a las familias

que reconoce con criterios de universalidad y derecho subjetivo las ayudas por nacimiento y adopción en estos años hemos incrementado

han tenido una parte importante en los acuerdos presupuestarios que hemos llegado pero usted como yo sabe señora garrido que todavía no hemos

yo en cambio hay algo que todavía no he conseguido adivinar y es que usted miembro del partido popular

y su partido han gobernado durante muchos años en españa y en comunidades autónomas

cuál era el referente en políticas de apoyo a las familias en las que me podía fijar del partido popular para poder trasladarlas a euskadi usted y su partido han gobernado como le decía y

revertir las tasas de demografía para poder yo y poder implementarlas en euskadi para mejorar porque ustedes han gobernado en muchas comunidades autónomas y en el estado y me gustaría que me trasladara concretamente esas propuestas una vez demostrada su eficacia yo le agradecería muchísimo

usted se ha centrado en el decreto de conciliación para las familias vascas nosotros

hemos realizado ese decreto que es un decreto pionero que es un decreto innovador en el ámbito de la conciliación que está basado en un riguroso análisis técnico

aquello que es una competencia del estado le quiero recordar señora garrido porque esto es competencia

y en concreto como ustedes saben bien nosotros no podemos inmiscuirnos en esas competencias de permisos de paternidad

es lo que hay si ustedes hubiesen hecho durante sus mandatos lo que otros partidos en este momento en el gobierno han ido poco a poco haciendo pues a lo mejor estaríamos en otra situación relativa a los permisos pero como no han hecho los deberes y nosotros sí que creemos sinceramente que necesitamos avanzar lo que hemos hecho ha sido

en esta iniciativa pionera con un esfuerzo económico muy importante para que podamos alcanzar esa igualdad entre las mujeres y los hombres porque sí realmente lo que es discriminatorio

no pueda tener los mismos permisos que mi marido a la hora de poder tener esta

por primera vez hemos planteado en este debate una serie de medidas concretas

y vamos a hacer una importante inversión somos el primer gobierno

en experiencias de los países más avanzados en materia de políticas demográficas y estamos consiguiendo algo que ya considero fundamental que es sensibilizar a la sociedad generar una nueva cultura y cambiar los hábitos en favor de la igualdad y la conciliación tenemos que volver a aclarar en la pregunta que me hacía en concreto que no estamos regulando permisos de dieciséis semanas a disfrutar por los padres sino porque estos permisos solo los puede regular la seguridad social

una ayuda complementaria de ocho semanas adicionales a las actualmente establecidas dentro de lo que es la seguridad social para los permisos parentales y estamos subvencionando excedencias voluntarias remuneradas para el cuidado compartido de hijos y de hijas y repito que

discriminatoria si me permite señora kortajarena es la actual situación en la que se encuentran demasiado a menudo

que ahora solo las mujeres se vean marcadas en sus trayectorias profesionales por ser madres porque

desde los primeros meses de vida para generar los mismos vínculos que hasta ahora solo se crean entre madres y bebes

a los bebes en su primer año de vida por un lado y también sensibilizar al mundo empresarial y a las mujeres trabajadoras de que la crianza

para poder recibir esta remuneración de estas excedencias voluntarias para la conciliación y la crianza se van a tener que cumplir una serie de requisitos son unas ayudas y que por tanto

buscando esos dos objetivos la conciliación y la igualdad y vamos a actuar con rigor a pesar de que

críticas por parte de ustedes y de otros grupos políticos para cumplir esos incrementos

esos objetivos que como le repito son importantes y es el objetivo a la igualdad y el objetivo de la conciliación

sobre lo que debería ser un elemento para avanzar en clave de consenso y eso lo comparto con usted lo que tenemos es muchas dudas informes

los posibles problemas tenemos un decreto que no parece que esté construido sobre demasiadas bases si las condiciones pueden cambiarse de una semana a otra tenemos falta de coordinación entre departamentos que hace que las condiciones en el ámbito privado y en el publico sean diferentes y tenemos situaciones que no se van a resolver como que las ayudas se van a pagar a la finalización de la excedencia y eso genera

usted ha conseguido una cosa en esta semana que es muy difícil y es que todos los titulares del mismo día sean recula rectifica y corrige

hay que ponerse un poco las pilas y espero que en esto sinceramente no quiera mirar no quiera dejar recomendarse por las políticas del partido popular

cuando yo le decía a la señora garrido cuál era su modelo no era para copiarlo sino para cuál era su modelo

todo aquello que sea positivo nosotros lo analizaremos para incluirlo en nuestras políticas

a su partido este decreto ha sido hecho con un gran trabajo técnico realizado con mucho rigor por parte de los técnicos del departamento

con los sindicatos y con la patronal y de verdad no improvisamos ni damos bandazos lo que hemos hecho ha sido intentar dar una solución a un problema que tenemos en euskadi ante un reto demográfico que nos hemos planteado innovando en políticas

país ni en comunidad autónoma hemos conseguido encontrar para poder poner en marcha que tenemos por tanto que establecer una serie de requisitos para intentar favorecer al mayor número de familias en euskadi

lo hemos hecho con el consenso y con el apoyo técnico viendo cuáles eran aquellas cuestiones que teníamos que abordar sobre todo la conciliación y
la lucha contra la brecha de igualdad eskerrik asko

gracias señora presidenta señora otamendi permítame recordarle el contexto se ha estado hablando durante mucho tiempo

de la nueva burbuja inmobiliaria de incrementos de los precios en el conjunto de españa

en los últimos cinco años lo que da una media de un diez por ciento anual

refleja una foto real de lo que ocurre en nuestro país con respecto a los precios de alquiler porque se basa en las fianzas de los contratos depositadas obligatoriamente lo que nos dice la ema es que el incremento medio de los de más de cuarenta y seis mil alquileres de viviendas colectivas registradas fue el uno coma ocho por ciento

y del cuatro por ciento en el año dos mil dieciocho con un ipc en esos años del uno coma uno por ciento

y del uno por ciento en el dos mil dieciocho por eso ateniéndome

teniendo en cuenta el contexto y la evolución general de los alquileres creo que la expresión que utilicé una tendencia creciente pero moderada

a la realidad de los datos eskerrik asko arriola jauna

lo que le puedo garantizar es que el trabajo se ha hecho utilizando

nosotros tenemos un registro donde se depositan las fianzas y estamos hablando ya de más de cuarenta y seis mil viviendas que tenemos registradas y que

de esas fianzas depositadas hemos llegado a los datos que concluimos no nos estamos inventando nada esta es la realidad le gustará más le gustará menos estará

el nivel de cercanía de los datos a la realidad es

esto es así le tengo que decir una cosa nosotros sabemos que trabajo por hacer en el ámbito de la vivienda y sabe usted que estamos impulsando desde el departamento todas las políticas que está en nuestras manos para desarrollar las políticas sobre todo de vivienda en alquiler nos preocupa el problema que tienen muchas personas y muchas familias para poder acceder a las viviendas y por eso

sabe usted que estamos impulsando promociones de vivienda en alquiler que a día de hoy tenemos ya

que somos la segunda comunidad a nivel de españa en promoción de vivienda protegida

pero que somos la primera comunidad en promoción de vivienda pública en alquiler son los datos del ministerio

para ponerlas a disposición de la ciudadanía que necesita acceder a la vivienda tenemos a día de hoy más de seis mil viviendas están los programas bizigune y asap estamos creciendo permanentemente

el gobierno tenemos un parque público mayor de catorce mil viviendas

de alquiler público en euskadi y en paralelo

que estamos desarrollando y que queremos impulsar y modificar lo que haga falta para que sea más efectivo a día de hoy sabe usted que más de

en la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda hemos activado el derecho a la vivienda derecho subjetivo hoy en día más de cinco mil preceptores

y lógicamente sabemos que queda mucho por hacer y que tenemos que afrontar este problema de forma

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea el veintisiete de junio de dos mil diecinueve en este parlamento se aprobó por unanimidad la ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales en la que se limitaba

en la periferia de las ciudades el día anterior a la aprobación de dicha ley el veintiséis de junio y tratando de evitar sus efectos el gobierno municipal de hondarribia concedió mediante decreto la aprobación inicial

ante esta situación señor arriola qué medidas va a poner en marcha el gobierno vasco para velar por el cumplimiento del mandato legislativo

agilización de la tramitación del proyecto por parte del equipo del gobierno municipal de hondarribia mila esker eskerrik asko

gracias señora presidenta señora garcía yo estoy seguro que usted

tanto como yo me sorprende por eso

una actuación realizada por un ayuntamiento dentro de sus competencias

porque ya sabía de antemano la respuesta este departamento no puede hacer nada

para hacerlo los municipios en este caso

son competentes en planificación y gestión urbanística y tienen plena autonomía para tomar las decisiones en esta materia respetando la legalidad vigente

señor arriola hay que recordar que llevábamos más de tres años sin ningún límite legal para restringir la apertura

de inseguridad jurídica y que fue una iniciativa impulsada por elkarrekin podemos y por los grupos de la oposición ante la inacción de los partidos que sostienen al gobierno

de los ayuntamientos a hacer centros comerciales desproporcionados en las áreas centrales de sus municipios como bien sabe

va en contra del interés general de la sociedad no solo porque no favorece al comercio de proximidad y fomenta un modelo

sino fundamentalmente porque el impacto de estas grandes áreas comerciales

contra la sostenibilidad económica social y medioambiental de los municipios donde se construyen o amplían y perjudica claramente a quienes viven en ellos

tramitó la aprobación con toda urgencia permitiendo que la empresa

una inversión de más de ciento treinta y tres millónes de euros que tendrá casi

doscientos espacios comerciales al servicio de las franquicias que contará con plazas de aparcamiento

sin duda multiplicará los problemas en una zona que ya de por sí

en vías de extinción entre otros efectos negativos este proyecto generará por tanto los efectos que se pretendían evitar establecimientos comerciales y no solo lo décimos nosotras desde las diferentes agrupaciones de asociaciones por el comercio de proximidad

son unánimes al decir que estos modelos destruyen el doble de los empleos que crean además hay que añadir que zaldunborda está en las faldas del monte jaizkibel el proyecto supondría la destrucción

que protege la red natura dos mil explíqueme señor arriola por qué los partidos que apoyan al gobierno aparentan defender al pequeño comercio ante los focos del mientras que con nocturnidad el día anterior a su prohibición aprueban un macrocentro comercial

y además con el impacto medioambiental que eso conlleva lo que supone situar los intereses económicos privados por encima de la voluntad democrática de esta cámara legislativa

tomen medidas piensen en la ciudadanía y paralicen un proyecto que generará

y económicas tan negativas para las vecinas y para el comercio local el mismo ustedes han puesto ahora en marcha una campaña para promocionar y para que no se extinga el comercio de proximidad pero este dinero se desperdicia

porque fomentan realmente el cierre del comercio local si queremos fomentar el comercio de proximidad lo que tenemos que hacer es cumplir una ley

de que en cuanto al límite legal para la instalación de nuevos centros comerciales haya habido una inacción de los partidos

usted lo sabe o lo debería de saber que no es así y le agradecería que lo reconociera

unir la ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales con

aparente o no aparente defensa del pequeño comercio es el peor favor que puede hacer usted en esta tribuna al pequeño comercio mire usted por dónde

que se aprobó como usted ha reconocido aquí por unanimidad en esta cámara

y supedita la implantación de estos centros comerciales al interés general expresado en este caso por los impactos en ordenación territorial y en el medio ambiente pero la propia ley basándose en los principios de no retroactividad de las normas y de seguridad jurídica

que usted creo que no conoce pero lo debería de conocer ya que su grupo participó activamente

así su disposición transitoria señala que las disposiciones de esta ley no son de aplicación a los planes urbanísticos que hayan sido aprobados provisionalmente

antes de la entrada en vigor de la misma la ley como usted sabe entró en vigor el diez de julio al día siguiente su publicación

que revisó las normas subsidiarias y habilita el uso de la actividad económica en el ámbito

se aprobó definitivamente en junio del diecisiete y el plan parcial que establece la ordenación

se aprobó inicialmente antes de la entrada en vigor de la ley el día anterior a su aprobación por este parlamento en consecuencia y según la disposición transitoria no le son de aplicación las limitaciones que introduce la ley

se ha argumentado que la aprobación del plan parcial se ha hecho con falta de transparencia con premura con la intención deliberada de adelantarse a la ley lo que impediría en su caso podido llevar a cabo la construcción de este macro outlet previsto

si esto es así efectivamente la cuestión debería dilucidarse en otros ámbitos sobre todo el municipal y por parte

hay cosas que a uno le pueden gustar más gustar menos o nada

pero esto no va de gustos sino de respetar el marco legal y actuar dentro de él y por ello en este momento cumpliendo precisamente con el mandato legislativo el gobierno nada puede hacer

actual sistema de gestión de comedores y referirme también después

al sistema alternativo al sistema complementario que habría que poner para dar respuesta

el sistema de gestión directa ha quedado en entredicho

por toda la comunidad escolar y por lo tanto no tocar ese sistema que tenemos a día de hoy en vigor no es una opción es cierto que ha sufrido retoques o parches los tuvo en dos mil diez como ya dijo el señor pastor

parciales con una participación parcial de la autoridad vasca de la competencia los tuvo en dos mil quince y en principio supuestamente los va a tener ahora

incluso con esos retoques y esos parches a día de hoy tenemos un sistema que es restrictivo que es opaco que es conflictivo que no educa que no es saludable que debiera y que no permite participar a la comunidad escolar en su gestión por lo tanto necesita cambios

cambios profundos y cambios urgentes nos atreveríamos a sugerirle que recogieran las recomendaciones que aparecen en el dictamen de la comisión de investigación donde se dice

basado en criterios objetivos y transparentes y estable que debería incrementarse la transparencia en la licitación del sistema a través de anuncios previos que deberían

adecuadas y proporcionales en los pliegos de contratación y que además se debería mejorar el control y seguimiento de los contratos pero como digo

un nuevo sistema complementario la propuesta que hicieron ustedes desde el gobierno vasco en enero del año pasado nuestro grupo considera que no es viable jurídicamente

es muy cuestionable que se puedan subrogar las monitoras a unas ampa

si no han recibido una adjudicación previa a ese sistema por parte de la administración

ceder el personal de cocinas o incluso las instalaciones a una entidad privada que no haya sido adjudicataria previamente el servicio y además creemos que el sistema que propusieron ustedes

ni establece una financiación estable que a día de hoy en todo caso se ligaría a una línea de subvenciones y además aboca

terriblemente difíciles de superar como los impagos las compras los suministros

por lo tanto nuestra propuesta seria que retirasen ese sistema alternativo

sistema alternativo para iniciar conversaciones con todos los agentes educativos sociales

su interés por desarrollar un sistema

complementario complementario por qué complementario porque tiene que tener una serie de características similares al sistema actual

que es lo que no hacia el sistema alternativo que proponían ustedes de ceder la gestión a las ampa mantener el carácter público

un sistema que debe ser público y también el personal debería seguir siendo público tendría que ser un sistema que también siguiera siendo supervisado por la administración la administración no puede ceder

debería seguir siendo cofinanciado y cuando digo cofinanciado no es subvencionado sino cofinanciado por las familias y por el departamento de educación y que además los escolares que estuvieran en ese sistema tuvieran su régimen de becas igual igual que el resto

y además debería de ser un sistema transparente donde los criterios de adhesión de los centros adhesión voluntaria y los criterios de contratación

hasta aquí las similitudes con el sistema actual por eso reitero

con unas diferencias claras con el sistema de gestión directa la primera de ellas es evidente tiene que ser un sistema descentralizado que permita una cierta autonomía a los centros tiene que ser obviamente en ese sentido un sistema participativo donde participe toda la comunidad escolar pero también aquellas instituciones locales implicarse en la gestión y también aquellos agentes económicos y sociales que estén interesados en impulsarlo tiene que ser también un sistema innovador y educativo que

y también en comportamientos cívicos y tiene que ser un sistema responsable social y ambientalmente que ayude a mejorar la calidad

a enraizarlo en un tejido económico y productivo local beraz

gaurko sistema dagoen moduan uztera eta denbora alferrik pasatzen uztera para llegar a un acuerdo señora consejera

buscar el consenso tanto con los agentes educativos como con los agentes sociales

tratar de llegar a acuerdos entre instituciones dentro del gobierno usted sabe que tiene al departamento de agricultura deseoso de poner en marcha planes de desarrollo rural para

de la obesidad infantil tiene usted a ayuntamientos dispuestos a apoyar nuevos proyectos en materia de comedores lo hemos visto con los proyectos pilotos que se

es decir tiene usted a día de hoy la disposición de todo el sector

y tienen ustedes la oportunidad de acometer estos cambios aprovechen esta oportunidad aprovechen esta disposición y aprovechen esta capacidad y cierren
un asunto que lleva ya muchos años coleando encima de la mesa tanto del gobierno como de esta sociedad eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

sailburuok legebiltzarkideok egun on becerra jauna son muchas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de comparecer ante este parlamento para informar en torno a la gestión de los comedores escolares siendo prolijas y detallas las explicaciones que hemos ofrecido desde el departamento de educación con absoluta y total transparencia desde el inicio de nuestra legislatura en la décima legislatura esto es desde a finales del año dos mil doce

tal y como trasladé entonces comenzaré recordando que el servicio de comedores escolares comenzó a prestarse en el curso noventa y siete noventa y ocho

hoy en día son más de noventa mil los menús que se sirven diariamente en la red pública y en la actualidad reciben ese servicio más de quinientos centros escolares

y el resto con la denominada comida in situ los números han cambiado porque la sociedad ha evolucionado

y sin duda podremos estar de acuerdo que debemos adecuarnos y orientarnos a esas demandas y en ello estamos me gustaría recordar estas cifras para dejar claro que bajo el concepto reduccionista del modelo de servicio único se engloba un servicio

complejo y con múltiples factores y variables a tener en cuenta por encima de todo debate y cuestionamiento la prioridad del departamento ha sido y es en todo momento prestar el servicio bajo la premisa de atender a la salud y bienestar de nuestro alumnado dando respuesta a su vez

que incluye dietas especiales atención a alergias intolerancias alimentarias etcétera

sino de un servicio definido a medida y específico de sus necesidades que se ejecutan como les digo en un escenario complejo jantokien kudeaketa ereduaren inguruan

hablamos de alimentación escolar sana y sostenible pero yo además incorporaría los ingredientes de calidad de cercanía y con todas las garantías de seguridad alimentaria

en las jornadas de alimentación escolar sana y sostenible celebrada la semana pasada y que este departamento ha inaugurado y participado hemos trasladado nuestras reflexiones no somos ajenos y entendemos de la misma manera la creciente concienciación y sensibilización de nuestra sociedad como sociedad madura y avanzada

aunque parece que no interesa poner el acento en ello no sea que se acaben los argumentos para señalar constantemente a este gobierno

por una parte que cuando accedimos al gobierno nos encontramos con un contrato de comedores un contrato que estaba en vigor y que lo modificamos en la primera oportunidad que tuvimos para ello y por otra parte que esa modificación de los pliegos de contratación ha sido avalada por la autoridad vasca de la competencia un organismo que por lo visto hay que tener muy en cuenta

valora positivamente las decisiones tomadas por esta administración

por parte de algunos así que creo que es conveniente recordarlas de vez en cuando eskerrik asko

dice usted señora consejera que esta sociedad ha cambiado y no puedo menos que coincidir con usted de manera que mantener el mismo sistema

sí lo tenemos es decir la orden que es del año dos mil creo que es de gestión de los comedores dice que el sistema de gestión directa es el único

que contempla educación de gestión de comedores entonces sí tenemos un único sistema estandarizado y la sociedad ha cambiado pero el sistema

pues mucho menos comparto también con usted que es un servicio complejo cómo no

a los centros educativos nos preocupa a nuestro grupo pero no se puede seguir abanderando la salud y la seguridad educativa de este sistema frente a los demás es decir el sistema de cocinas el sistema in situ no es más inseguro

ninguno de ellos tiene por qué tener ningún problema si se realizan correctamente entonces apelar a mantener el sistema sobre la base de la seguridad alimentaria no sé

ahora mismo es simplemente un escudo que utilizan ustedes para no afrontar el resto de cambios no son más seguros los huevos traídos de segovia

que los huevos que se puedan producir el larrabetzu per se tiene usted al lado a la consejera de salud

entonces sabiendo que es un servicio complejo pues admitimos que la solución también es compleja

esas soluciones y no es suficiente que ustedes digan no vamos a obstaculizar a quienes quieren otro modelo porque quienes quieren otro modelo no son competentes en ponerlo en marcha

a esos otros sectores que quieren otro modelo sino en que ustedes lideren la búsqueda de ese otro modelo y que la lideren de una forma un poco diligente porque llevamos

y no tenemos otro modelo todavía complementario como le hemos dicho y el debate no está solamente en ese modelo complementario al que usted se ha referido que no pondrían obstáculos sino que también el sistema que tenemos hoy en día hace falta seguir modificándolo

en dos mil doce lo hicieron también es cierto que la autoridad vasca de la competencia dijo que no todas sus recomendaciones habían sido tenidas en cuenta lo dijo la autoridad vasca de la competencia no la anterior presidenta la actual y en dos mil quince sí le hicieron caso

la cuestión es que a día de hoy sigue estando en manos de siete u ocho empresas sigue siendo restrictivo el porcentaje de financiación de las familias

sigue siendo el espacio más conflictivo de todo el entorno escolar el momento del comedor es el momento donde más casos de bulling se producen

un modelo relativamente poco saludable el catering en caliente que es el modelo no voy a decir hegemónico pero sí mayoritario a día de hoy en el sistema de gestión directa el catering en caliente hace que la calidad nutricional de los alimentos

en tres horas se reduzca a la mitad nuestros escolares se comen ese menú a las siete horas y no permite participar a la comunidad escolar no les permite ser parte de la elección ni de la empresa ni del modo de gestión y esto también es un signo de que la sociedad ha cambiado la gente quiere participar la comunidad escolar quiere un sistema educativo descentralizado y yo sé que ustedes cuando hablan de un nuevo sistema educativo hablan de la necesaria descentralización del sistema educativo

no podemos considerarlo solamente como un servicio adicional como si fueran las extraescolares que también por cierto son parte del sistema educativo

de ese todo integral que es el sistema educativo comedores y espacio docente y por lo tanto le animo a que no tengan que esperar ustedes a debates agrios

si la actitud que toma el departamento es la de colaborar

señor becerra se lo voy a decir más claro ninguno de los expedientes que hemos tramitado desde el departamento desde que soy consejera

sino todo lo contrario avalados por la autoridad vasca de la competencia repito ninguno de los expedientes que hemos tramitado desde que soy consejera ha sido cuestionado dicho esto y siguiendo un poco en la línea de lo que usted ha traído hoy aquí

este parlamento como le he indicado en mi primera intervención tenemos un conjunto de propuestas

de los centros y su alumnado y las demandas de nuestra sociedad nuestra primera apuesta es reforzar el papel del servicio de comedor y las implicaciones que la alimentación tiene en otros ámbitos

garantizando un servicio inclusivo e igualitario sin olvidar su calidad y seguridad seguimos impulsando y extendiendo la iniciativa comedores saludables en permanente mejora continua

modelos de alimentación saludable para ello se está incrementando la fruta y la verdura en los menús

por los productos de cercanía y la dinamización de la economía local además de iniciativas desde educación infantil que entiendan el proceso de nutrición desde el origen en el ámbito de la formación profesional como le he citado antes también estamos desarrollando experiencias en torno a la economía circular la economía circular que aporta una nueva perspectiva a la economía sostenible en resumen estamos con ilusión por seguir trabajando y mejorando y estoy convencida de que las diferentes posiciones los diferentes puntos de vista van a sumar como hasta ahora estamos abiertos

pongamos sobre la mesa la comisión de seguimiento se mantiene permanentemente abierta como foro de debate de las distintas alternativas que nos traigan los agentes implicados pero siempre

corresponsabilidad y bajo la premisa de prestar un servicio público de calidad y sostenible que nos permita mejorar el bienestar de nuestro alumnado

ahora mismo el sistema educativo vasco mantiene la gestión ordinaria una gestión centralizada pero sigamos trabajando y analizando otras posibles opciones el debate y la reflexión deben ser permanentes y estoy segura que dará sus frutos en línea con esto que comento

que pudiera permitir explorar otras posibilidades evidentemente estas opciones deberán contar con el aval jurídico necesario pero es una opción en la que estamos trabajando y que veremos si en un medio plazo nos puede abrir otras posibilidades

aportando colaborando e impulsando debates constructivos los debates interesados tienen un corto recorrido
cada cual que decida cuál es su posición eskerrik asko uriarte anderea

conocimos la noticia parece ya que definitiva que se va a proceder por parte de osakidetza al cierre de pac

la verdad es que los vitorianos hemos recibido esta noticia con sorpresa e inquietud yo creo que es algo entendible cuando en vitoria

de usuarios y de pacientes además a cada uno de ellos muy determinado eso va

el pac de olaguibel tenemos desde el grupo popular primero

esta decisión y sobre todo no nos queda claro y es la razón por la que hemos formulado esta pregunta las razones que han llevado

de san martin además un servicio muy valorado por los vitorianos

del pac de olaguibel que ya de por sí en periodos concretos está bastante colapsado

de la gripe y por otro parte si ustedes también han tenido en cuenta el impacto que esto puede suponer en las propias urgencias de txagorritxu

señora consejera la pregunta es muy concreta qué criterios han llevado a su departamento a cerrar de forma definitiva
san martin en vitoria gasteiz eskerrik asko

ante un posible brote de gripe aviar y como medida de refuerzo oskadietza decidió reforzar el pac de olaguibel con la apertura con la apertura exclusivamente los fines de semana del centro de salud de san martin

como parece lógico en un proceso continuo de reorganización se ha revisado la estructura y los datos de actividad y la conclusión es que no es eficiente mantener dos estructuras similares durante los fines de semana concretamente la atención en el pac de olaguibel es posible también mejorar en este la asistencia así de sencillo señora garrido

la prestación sanitaria de los vitorianos y vitorianas y hacer una gestión más eficiente de los recursos públicos eskerrik asko eskerrik asko

pues señora consejera tengo que decirle que no se ha entendido la decisión pero a tenor de su respuesta

respuesta sigo sin entender la decisión y me imagino que es algo compartido por miles de vitorianos que acuden al pac de san martin no entiendo

dio este servicio como una medida de refuerzo en el año dos mil diez a propósito de una crisis concreta

no entiendo la provisionalidad durante nueve años por lo tanto creo que la razón no está justificada si es esa porque un servicio provisional durante nueve años pues es demasiada provisionalidad suena más bueno suena más a recortes señora consejera y suena más a que bueno pues ustedes lo quieren vestir este recorte supuesta o pretendida reorganización de la asistencia sanitaria en álava que va a beneficiar a los vitorianos pero a raíz de las explicaciones que nos ha dado usted aquí no veo dónde vamos a mejorar la asistencia sanitaria los vitorianos

se van a poner en marcha en el pac de olaguibel no me ha dado una respuesta al tema de la saturación yo he visitado los dos pac usted no es de vitoria pero me imagino que como consejera y dado la responsabilidad que ostenta actualmente antes de tomar esta decisión habrá procedido a hacer una visita hombre

es muy significativa y muy ejemplar de lo que puede ser el pac de olaguibel y el pac de san martin en pleno funcionamiento cuando tenemos los episodios de la gripe pero

está bastante lleno las salas de espera el espacio es muy pequeño no se si ustedes han previsto cómo van a arbitrar toda esa posible más demanda que va a llegar al pac de olaguibel y me gustaría que hablara en la segunda intervención de los refuerzos que se

en el pac de olaguibel si van a proceder a alguna reforma

y también no me ha respondido a qué va a pasar con las urgencias de txagorritxu porque habrá mucha gente que opte
por las urgencias de txagorritxu y de paso también me imagino que habrá sido una actuación coordinada con el ayuntamiento qué va a pasar con los aparcamientos en la zona de olaguibel que también puede haber problemas en esta materia eskerrik asko

además nos ha permitido implementar una serie de mejoras para ellos y para los usuarios destacaría que el número de profesionales sanitarios

y adicionalmente hemos ampliado el horario del servicio de las áreas administrativas asimismo estos cambios nos han posibilitado

profesionales de atención primaria añadiré para que no existan dudas que estas medidas de unificación se han tomado también en base a datos objetivos el seguimiento que se ha realizado nos permite afirmar que este cambio organizativo exclusivo de los fines de semana

es decir la unificación de la asistencia sanitaria de san martin

ningún recorte permite una mejor gestión de la demanda y de los recursos profesionales y materiales además supone contar con un centro en el que se facilita la organización

mejor organizado con capacidad docente con mayor capacidad resolutiva y por lo tanto mejorando la calidad asistencial para

alaveses aprovecho también para recordar a todos que el horario del pac se mantiene y que todos buscamos atender

la mejor organización y dar respuesta a las necesidades de la población de vitoria eskerrik asko eskerrik asko

consejera y consejeros compañeros y compañeras parlamentarias

sus prestaciones sus recursos y sus infraestructuras y los esfuerzos de su gabinete de comunicación que

se pueden empañar por la percepción de algunas poblaciones que están notando que la calidad de la prestación que están recibiendo esta resentida hemos tenido dos casos puedo traer más casos porque han pasado ya ciento y pico días desde el último control y entonces se acumulan los problemas que vienen del verano pero bueno los dos casos rápidos que

la ausencia de anestesistas en algunos hospitales comarcales en concreto hospital de mendaro que viene ya desde febrero

ha ocasionado que listas de espera como de cataratas se ha triplicado y algunos procedimientos como las colonoscopias se han demorado

que los vecinos y vecinas han comprobado cómo se reduce la plantilla

de sus médicos de familia a la mitad e inclusive

a la mitad y otra plaza no tiene sustitución son dos casos que nos preocupan porque pueden alterar

y los esfuerzos que me consta la consejera y su equipo están haciendo por qué pasa esto eskerrik asko

legebiltzarkideok sailburuak no se lo voy a negar señor uria en momentos puntuales y en centros concretos tenemos problemas es cierto que tenemos dificultades para contratar

especialidades médicas y quirúrgicas esto ocurre aquí ocurre en el conjunto del estado y les ocurre en todo europa y esa dificultad para contratar anestesistas por la que usted ha preguntado y también digestivo supongo

ha provocado que la demora media para la cirugía de cataratas en concreto

se haya incrementado y claro que tomamos medidas no tenga ninguna duda que el sistema sanitario vasco esté considerado como uno de los mejores sistemas a pesar del gran incremento de indicaciones de cirugías

y los problemas que tenemos para captar porque no hay profesionales de determinadas especialidades es un gran reto de gestión

estar donde estamos es un claro ejemplo de ese esfuerzo de gestión que realizamos a diario respecto a la cirugía por la que usted pregunta y que le preocupa lógicamente le puedo confirmar

y la reincorporación de un profesional que disfrutaba de una baja maternal ha permitido que la situación se esté resolviendo eskerrik asko

eskerrik asko erantzunagatik gracias por la respuesta

ya sabíamos que iba a pasar esto ya sabíamos no por decir lo que pasa no por decir qué problemas hay

más de diez años dirigentes de osakidetza planteaban que íbamos a tener problemas

con la plantilla y con la gestión de personal hay autores que plantean que no es un problema de falta de médicos es un problema de plazas poco atractivas

pero no solamente este trabajo se propusieron inclusive varios asuntos traer

más de mil médicos jóvenes están en el extranjero vascos traer y homologar médicos del extranjero reducir guardias aumentar retribuciones y sobre todo

hacer atractivas las condiciones de trabajo el escenario no es para menos

quince especialidades a pleno empleo treinta y cuatro por ciento de empleo precario entre solamente médicos

la edad media se dispara más de cincuenta años si es un problema de atractivo laboral

por qué tienen que pasar estos problemas creando en la población percepciones

nuestra capacidad de trabajo en osakidetza algunas

y de las plataformas ciudadanas de eibar de mendaro de zaramaga del otro lado de plentzia por qué tiene que pasar esto si sabemos

pleno empleo anestesia radiología y urología pleno empleo si sabemos cómo están las cosas

pero también sabemos que no faltan médicos están se han presentado a las ope eskerrik asko uria jauna bukatu zaizu denbora

como un sistema que debe ser capaz de dar respuesta al conjunto de la sociedad vasca con equidad euskadi es además un país

lo que nos permite gestionar nuestros recursos de una manera bastante ágil y en este aspecto resaltaría el compromiso de nuestros profesionales así

que podría ser un área como usted ha llamado de difícil cobertura o poco atractiva dos profesionales del hospital universitario donostia se están desplazando dos veces por semana tanto para pasar consulta como para llevar a cabo actividades quirúrgicas

nos apoyamos entre centros cuando lo necesitamos es decir gestionamos nuestros recursos y ponemos en marcha las medidas necesarias para solventar aquellas situaciones que en cualquier empresa o sistema sanitario ante un déficit de profesionales se pueden generar

por ejemplo en la adecuación de los espacios físicos necesarios para poner en marcha la consulta única

y hacer más eficiente los recursos propios de esta osi y también trabajamos y se va a llevar a cabo el incremento de la actividad semanal con un quirófano adicional esan bezala neurriak jarri dira

legal marco regulatorio como se ha contestado con anterioridad en este mismo pleno el gobierno vasco respetará como no puede ser de otra manera la ley de instituciones locales de euskadi una legislación que dota a los municipios vascos de un marco jurídico con amplio margen de autogobierno para regular y atender las demandas de la ciudadanía en su condición administración más próxima a ellas

el gobierno tendrá que respetar le guste o no no se trata tanto de gustar o no sino de respetar la ley

y veremos cómo evoluciona y cuáles son los detalles de este proyecto que aún están por conocer

anticipar que estamos en contacto con las asociaciones de comerciantes para recoger sus inquietudes y articular medidas de refuerzo al comercio local eskerrik asko

mire decir que el gobierno va a respetar la legalidad y que si esto respeta la ley puede salir adelante es pura tautología es no es política eso es decir que

que yo respeto e incluso he practicado en algunos momentos pero no es el caso la cuestión no es si es legal o no es legal

es si esto es bueno o es malo para el pequeño comercio y eso se tienen que posicionar

que no está ni siquiera en el ámbito territorial de nuestras competencias y hemos hecho decenas incluso centenares de iniciativas cómo me puede decir que hay que respetar la autonomía municipal en este ámbito cuando el proyecto sus efectos trascienden con mucho el ámbito territorial

cuando un ayuntamiento va a hacer algo que va a destrozar el comercio del entorno fuera también de ese área municipal y que va a provocar afecciones medioambientales y del transporte fuera de ese municipio hay que intervenir hay que intervenir políticamente ya sé que jurídicamente el caso es complicado

pero ustedes no se van a poder poner de perfil no se van a poder poner de perfil en este tema ustedes van a estar

si eluden la responsabilidad que recae sobre ustedes aunque sea por omisión ustedes estarán favoreciendo el proyecto

con una llamada de teléfono del señor lehendakari al alcalde de hondarribia para decir que deje esta pasada a un lado con una llamada de teléfono y a esto tenemos que contribuir todos tenemos que contribuir todos y todas y usted también usted no puede hacer una campaña a decir

y ponerse de perfil usted no puede decir que el comercio está en vías de extinción como están diciendo ya los anuncios y pasearse con el principal depredador debajo del brazo

y omitir su deber de hacer frente al proyecto de zaldunborda sé que es un debate incómodo es un debate incómodo para su partido yo

le he escuchado al consejero y el otro día escuché su posición en el debate pero le aseguro que no les vamos a permitir que se pongan de perfil o están en contra de zaldunborda

para el comercio y es un tema que en la localidad evidentemente en hondarribia fuera de la alcaldía y del partido nacionalista vasco genera un rechazo unánime y también en irún y en el entorno y tiene efectos que van

a comisión una proposición no de ley vulnerando mis derechos como parlamentario para decidir en qué marco se van a hacer los debates intentando poner sordina a un debate importante pero yo le garantizo

sordina que este debate va a ir hasta las últimas consecuencias y hasta que seamos capaces de parar este proyecto

que con la ley que habíamos hecho estaba claro cuáles eran nuestros objetivos y creía que compartíamos objetivos pero si ustedes no se activan y no digo prohibir porque no pueden prohibir pero si no se activan políticamente para impedir que sí lo pueden hacer
estarán ustedes colaborando con zaldunborda eskerrik asko casanova jauna

señor casanova siento diferir en una cuestión y es que sí es una cuestión de legalidad o no el gobierno no tiene competencia para paralizar este proyecto y usted sabe señoría que el gobierno formó parte del consenso que ha dado lugar efectivamente a la ley por la que se regula la apertura condiciones y características de los grandes establecimientos comerciales

y con un amplio sector de la sociedad y los pequeños comerciantes asociaciones y federaciones en que debemos reforzar y apoyar el modelo comercial de euskadi estamos todos de acuerdo

y a los fenómenos transnacionales que quizás son los más disruptivos es un proyecto del que todavía aún no conocemos

y además también le digo que lo que debe existir es una mayor concienciación del consumidor para mantener con actitudes de consumo responsable nuestro comercio tradicional y de proximidad esto

las administraciones debemos reforzar apoyar con campañas de ayuda esta semana también hemos aprobado en consejo del gobierno el programa de ayudas que aprovecho para mencionarlo

tanto para comerciantes que inician su actividad como ayuntamiento que desarrollen estrategias de implantación y posicionamiento en los entornos urbanos interviniendo no solo en los centros urbanos sino también en los barrios

hemos apostado además también por un refuerzo de la estructura de las asociaciones de comerciantes y además lo hacemos con formación y con programas destinados al pequeño comercio

pero como expresaba ayer los consumidores también tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir cómo y dónde compramos y dónde decidimos hacerlo

al comprar local hacerlo en el comercio de nuestros centros urbanos

en que el precio que no estamos pagando ahora quizás lo paguemos más adelante en un escenario mucho más precario efectivamente gracias eskerrik asko eskerrik asko

barrio jauna zurea da hitza sí buenos días señora presidenta
consejero consejeras buenos días a todos señorías

que esta iniciativa se podría haber realizado a través de una solicitud de información o alguna pregunta escrita y bueno hubiese estado bien

está bien si se hubiese cumplido la ley dos barra dos mil diecinueve en su totalidad

cuál era el grado de cumplimiento de la misma de las partidas aquellas de cultura de deportes que

que preguntarle al señor consejero sobre sus propósitos en relación con aquellas cuestiones

de febrero de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio dos mil diecinueve en materia de retribuciones y otros aspectos en la prórroga en el apartado

dos mil dieciocho durante el ejercicio dos mil diecinueve se ajustará el régimen establecido en el título nueve del texto refundido de disposiciones etcétera etcétera aprobado por el decreto

once de veinticuatro de mayo en particular se entenderán prorrogadas las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones que figuren nominativamente asignada

para el ejercicio dos mil dieciocho siempre y cuando no financien programas o actuaciones

debieran finalizar en dicho ejercicio bien a reglón seguido lo que sí hubo eso que podía ser una información

información precisamente de nuestro grupo donde le proponíamos que concretara las partidas prorrogadas y las que no y efectivamente

le solicitábamos relación individualizada de subvenciones nominativas correspondientes o incluidas en cualquier título o capítulo del presupuesto

en materia de retribuciones u otros aspectos relativos a la prórroga ya me

y un punto segundo en las que no van a ser objeto de prórroga para el ejercicio dos mil diecinueve y su concreto importe total bien

es esa se respondió las treinta y uno que sí iban a ser objeto de prórroga y las cuatro

de las que habíamos hablado en presupuestos que se habían negociado en el dos mil dieciocho se consideraban prorrogadas a través de esa ley que

mayoritariamente por esta cámara y nosotros así lo hicimos y esa es la cuestión estamos viendo que no se están cumpliendo en relación con algunas de las cuestiones pero usted

en octubre estamos en año es decir queremos saber queremos saber qué propósitos

general de la comunidad autónoma y que fueron prorrogadas por ley dos mil diecinueve y que se respondió que estaban efectivamente prorrogadas

medianas en relación con aspectos que tienen que ver con deporte con cultura

de su departamento en relación con estas cuestiones porque nos parece relevante que
lo que está en la ley se cumpla eskerrik asko barrio jauna

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukideok tal y como se expone

el departamento de cultura y política lingüística ya respondió por escrito el pasado mes de abril a una solicitud de información realizada por el señor barrio acerca de este mismo asunto por tanto

como no podría ser de otra manera va a tener como base la misma información escrita que remitimos a esta cámara hace seis meses la ley dos barra dos mil diecinueve de catorce de febrero de medidas presupuestarias urgentes dice usted

durante el ejercicio dos mil diecinueve se ajustará al régimen establecido en el título nueve

aprobado por el decreto legislativo uno barra dos mil once de veinticuatro de mayo y añade en particular se entenderán prorrogadas las autorizaciones de gasto

dos mil dieciocho siempre y cuando no financien programas o actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en dicho ejercicio de acuerdo con la ley y con esta disposición

al presupuesto del departamento de cultura y políticas lingüísticas hay una serie de partidas

que figuran por tanto con el mismo enunciado en el presupuesto prorrogado

un concepto del epígrafe que usted y yo hemos leído es que precisamente la citada disposición

las autorizaciones de gasto estamos hablando por tanto de que un departamento

y en ninguna parte aparece la obligación de utilizar esos recursos para el mismo fin para el que quedaron comprometidos en el ejercicio anterior

dicho esto señor barrio creo que en esta cámara todos y todas somos conscientes de que esas partidas nominativas

obedecían a un pacto presupuestario el pacto presupuestario que el gobierno ha alcanzado con su grupo

algunas partidas nominativas que no figuraban en el proyecto que el ejecutivo había remitido previamente a esta cámara en otros casos se acordó la ampliación de otras partidas ya contempladas las partidas acordadas con el partido popular e incorporadas al departamento de cultura sumaron un total de dos millónes quinientos cuarenta y cuatro mil euros entiendo que a usted le preocupen

esas partidas a las que estoy haciendo referencia fue mediante ese acuerdo presupuestario como ustedes convencieron al gobierno para que adoptara decisiones presupuestarias nuevas decisiones por tanto no contempladas inicialmente por el gobierno

el acuerdo al que llegaron con el gobierno fue una forma de hacer valer su representación en esta cámara fue una manera de hacer valer la importancia política de su sigla

a determinadas entidades colectivos e instituciones la capacidad de influencia del partido popular en esta cámara

pero señor barrio el año pasado en el momento crucial de la elaboración y aprobación del presupuesto ustedes cambiaron de opinión y eligieron otra vía para visualizar su importancia e influencia y decidieron sumar sus votos a los de podemos y eh bildu e impedir que el gobierno pudiera haber aprobado su presupuesto

gracias a las cuales hemos podido desarrollar las políticas contempladas

suscribieron para el inicio de la legislatura resultaría cuando menos sorprendente señor barrio

que supongo que presumiblemente se traducirá en una moción en las próximas semanas consideraría sorprendente que usted pretenda exigir al gobierno que prorrogue partidas de un acuerdo que ustedes decidieron no prorrogar

con el acuerdo de dos mil dieciocho como no podía ser de otra manera ejecuto las partidas acordadas y cumplió con lo pactado pero eso fue en dos mil dieciocho y ahora estamos en el ejercicio dos mil diecinueve y ahora esas partidas no son de obligado cumplimiento para el gobierno vasco ni desde un punto de vista legal

hemos hecho una lectura positiva de algunas de aquellas subvenciones nominales y en consecuencia hemos decidido ejecutarlas

en este dos mil diecinueve por considerar que están alineadas o son coherentes con la acción del departamento y del gobierno pero señor barrio en los casos

el gobierno puede cambiar y cambiara el destino de esos recursos si lo considera sin incumplir ninguna ley ni ningún mandato

ni usted ni su grupo pueden pretender sacar provecho político de un presupuesto que no quisieron negociar y que tumbaron con su voto

el grado de exigencia que su grupo parlamentario plantea con respecto a determinados intereses legítimos y que fueron incorporados en función de un apoyo puntual a un presupuesto no pueden ser revindicados

legales que en nuestra opinión carecen de sustento eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

vamos a ver señor consejero es una voluntad absolutamente negativa en relación con lo que fue aquellos acuerdos aquellos pactos que

se instalan en el tiempo y se prorrogan nosotros negociamos con el gobierno también la prórroga y cuando negociamos la prórroga negociamos el cumplimiento de esas partidas y por esos se puso lo que se puso señor consejero es decir tendremos que tomar medidas de alguna manera no sé usted también dice que no se cumple usted quiere que haga lo que quiera

o hará lo que quiera con ese dinero que formaba parte de una prórroga que era la negociación de la prórroga dígaselo al señor azpiazu qué pena que no esté en este momento se lo ha comentado

por eso se aprobó la ley dos barra dos mil diecinueve señor consejero por eso se aprobó y además yo creo que no estamos perjudicando al partido popular con esa actitud o con esta bueno no se llegó a ese acuerdo presupuestario pues no se llegó pero se llegó al acuerdo

funcionarios tuvieran sus sueldos y sus mejoras retributivas pero también para las partidas prorrogadas eso se hizo esa ley con esos dos conceptos tan claros o sea que es un incumplimiento señor consejero es un incumplimiento el hecho de ejecutar esas partidas en este nuevo

y no nos lo vamos a tomar bien yo le pido que haga una reflexión porque no estamos hablando de caprichos del partido popular no estamos hablando

a deporte femenino a cuestiones culturales a centros culturales a algunos centros de comunidades

forman parte de pequeñas actuaciones que bueno que benefician al partido popular y que benefician a personas

determinadas partidas a algún asunto que se esfuerzan por el balonmano femenino

ese es el elemento fundamental y es que además estamos en la política y usted ahora me va a pedir además

para leyes claro y usted me va a pedir apoyo para leyes estamos tramitando la ley de profesiones del deporte o vamos a tramitar la ley del deporte

tiene patrimonio documental archivos alguna cosa queda pendiente y usted me va a pedir apoyo para esas leyes

lo que usted mismo su grupo su gobierno ha aprobado hemos negociado con el señor azpiazu yo creo que tienen que reflexionar se lo he visto porque yo le he visto a usted

lo que era antes una actitud abierta y cercana y facilitadora

para dos mil diecinueve pero vuelvo a decir otra negociación tan importante

esta comunidad autónoma como es la de la prórroga hubo un acuerdo y

la negociación con el señor consejero de hacienda fue que se cumpliesen las partidas que se habían prorrogado

otros muchos departamentos del gobierno al que usted pertenece están ejecutando todas esas partidas y la autorización de gasto se ha cumplido la ejecución de esas partidas con el cumplimiento de esas partidas con la prórroga de esas partidas que también afectan a entidades a colectivos a personas con cara y ojos y lógicamente por eso

y además al gobierno le pareció bien negociarlas porque era interesante y en ese sentido lo volvemos a repetir es lo que hay que hacer vuelvo a decir en una actividad política parlamentaria por parte de los ejercicios que tenga que hacer el gobierno en relación con estas cuestiones pero me preocupa me preocupa esa hostilidad que hemos encontrado en este momento y yo le pediría que reflexionase es decir

vamos a tener una actitud amistosa por lo menos en relación con lo que puede ser constructivo
yo le pido esa actitud amistosa también muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

amigo barrio hostilidad ninguna no la verá usted donde no la hay

igual no me he enterado de que se ha negociado lo prórroga presupuestaria yo pensaba que las prórrogas automáticamente

si no había una nueva ley presupuestaria creo que si se intentó alguna negociación sobre leyes presupuestarias y creo que con escaso éxito en el caso de su grupo pero bueno pero hay una persona que sabe más que yo

con respecto al departamento de cultura y política lingüística el acuerdo que usted menciona el del dos mil dieciocho que no el del dos mil diecinueve

no han tenido reflejo en la prórroga al estar vinculadas a proyectos de carácter anual

el año dos mil dieciocho hay otras treinta y uno referencias que se figuran en el nominal o en el texto del acuerdo prorrogado algunas de ellas el gobierno como le he dicho las va a ejecutar y otras en principio no

aquel acuerdo que nos obligó a modificar criterios gubernamentales en algunas materias

de nuestro presupuesto la comisión parlamentaria correspondiente pues creemos que ustedes las han dejado en prórroga hay aspectos

para llegar a un acuerdo pero no me obligue a cambiar las prioridades cuando usted no quiere llegar a un acuerdo

tanto ustedes como nosotros hicimos en su día una valoración positiva del acuerdo presupuestario todavía estaríamos a tiempo de repetir ese acuerdo presupuestario y de incorporar por su capacidad de influencia y por su valor político

consideren necesarias al presupuesto pero eso depende de ustedes y de nosotros considero que el acuerdo se ha cumplido y creo que

fuera de una reclamación de legalidad el planteamiento que usted me está haciendo eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos tal y como señalo en la pregunta los ertzainas integrantes de la veintisiete promoción como colofón a su formación el pasado veintiséis de junio recibieron en el salón de actos de arkaute una charla a la que era parece obligatorio asistir usted me dirá si es así señora consejera impartida por

en primer lugar por qué solo esta asociación por qué otros sindicatos no pudieron impartir charlas a los alumnos en iguales circunstancias y la segunda es por qué esta asociación por qué se elige para dar esta charla a una asociación absolutamente ideologizada

una asociación cuyo objetivo es impulsar el sentimiento de pertenencia y de identidad de la sociedad vasca una asociación con una visión como digo identitaria del país vasco con reclamaciones políticas y que aboga entre otras cuestiones por la desaparición total de la presencia de la guardia civil y la policía nacional en euskadi

un centro que debe perseguir conseguir que nuestra policía tenga a los mejores agentes en la calle por ello queremos preguntarle señora consejera cuál era el objetivo de esta charla dónde está la función formativa de esta asociación

señaló que primaba el tema o la materia impartida por lo que cabe suponer

por tanto señora consejera cuál ha sido el motivo para autorizar dentro del periodo electivo la charla

eskerrik asko presidente andrea señora llanos me pide opinión sobre

de las actividades extracadémicas organizadas por el cuerpo docente de la academia al referirse a las personas que dieron la charla habla usted de eusko eta ertzain abertzaleen elkartea lo que no deja de ser una redundancia imagino que para

en cualquier caso sabe usted que se trata de una asociación legalmente constituida

recoja y abogue por la desaparición de la guardia civil o la policía nacional como usted señala

sobre el origen de la ertzaintza de los mikeletes de los forales de los miñones sobre la ertzaintza del treinta y seis sobre la ertzaintza de mil novecientos ochenta y dos de sus funciones de su historia de sus orígenes

borroka sufridos los veintitrés atentados que costaron la vida a quince agentes de la ertzaintza y dejaron secuelas graves en otros muchos en cualquier caso como le digo

extra académicas no evaluables que el equipo docente de la academia consideró oportuno y adecuado eskerrik asko

como asociación porque llegaron a decir que no que eran dos integrantes y yo quiero que vea aquí

su paso con el tiempo así como el motivo de la creación de nuestra asociación y con relación a la desaparición de la guardia civil estaba buscando en qué momento hicieron esas declaraciones pero las hicieron precisamente apoyando parte de sus peticiones

como asociación vestidos de uniforme y con todos los medios de la academia a su alcance tenemos entendido

a las distintas promociones con lo cual lo que le vengo a preguntar es si van a permitir

solicitado impartir estas clases de formación pues también intervengan

no de adoctrinamiento en qué ha contribuido esta charla a la formación de los agentes porque su departamento por lo que debe velar

porque esta sea cada vez más avanzada y porque los alumnos tengan mejores condiciones cada vez aunque en esto parece que van hacia atrás pero sin embargo parece que

y desde luego entre las funciones de la academia no debe de estar

ustedes vuelven a utilizar las instituciones a menospreciarla a utilizar a la academia a utilizar a la ertzaintza

diversa por mucho que ustedes intenten proyectar lo contrario le preguntaba

esta asociación a los alumnos claro en qué ha contribuido en imbuirles

nacionalista que es su objetivo ya sea directamente o ya sea a través de asociación interpuesta por lo tanto deben dejar de mezclar su interés político con su responsabilidad institucional

y mayores medios cada día velen porque los agentes salgan de arkaute con vocación de servicio y ayuda al ciudadano reforzada y no con un bombardeo político dirigido a establecer

discernimiento que tienen los alumnos y alumnas de la academia de arkaute si usted me dijera que solo hubo una charla formativa

me preocuparía como usted pero resulta que no que hubieron un total de quince actividades extra académicas no evaluables

así visitaron por ejemplo la asociación euskal gorrak estuvieron con personas con diversidad funcional y trastorno psiquiátricos

tuvieron otra charla sobre protocolo básico de verificación de documentos de identidad y de viaje

otra sobre juicios orales les hablaron sobre la orden de actuación policial con menores sobre la seguridad informática en los smartphone la cooperación policial en el sistema

sobre la diversidad afectivo sexual en los cuerpos de seguridad un encuentro con la asociación de alcohólicos anónimos dos horas con el catedrático jon mirena landa sobre delitos de odio y también un encuentro con ertzainas de la ipa la asociación internacional de policías

donde parece que solo ve una intencionalidad ideologizante como digo menospreciando la propia capacidad que tienen los y las alumnas

de todo el año participan diversos especialistas diversas asociaciones instituciones organismos sindicatos y cuerpos policiales por tanto

para mejorar la formación de estas personas de los agentes que serán los responsables de la seguridad pública de euskadi esa es la encomienda que tiene la academia y esa

visión orientada hacia la pluralidad la diversidad que es lo que es reflejo de nuestra sociedad y es a quien han de atender estos agentes eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta última pregunta del pleno de hoy señora consejera de seguridad hemos conocido por la publicación de un diario digital que

en el palacio de justicia de vitoria había sido citada la señora múgica compañera suya de partido compañera también de labores de gobierno porque ha sido alto cargo

en un procedimiento judicial que está investigando una serie de irregularidades en las oposiciones de osakidetza por las que precisamente ella fue cesada y que incluso llegaron

como la cita judicial se hizo pública pues en el acceso al palacio de justicia había una multitud de medios de comunicación gráficos profesionales de los medios de comunicación que esperaban sacar una foto o unas declaraciones de la señora múgica a la entrada o una valoración de su citación lo que fuera lo que ellos quisieran

no sé si compañero de partido amigo familiar lo que fuera un comisario de la ertzaintza que inmediatamente le pidió entrar por la parte de atrás por el garaje este comisario

cargándose todo el procedimiento de acceso a los palacios de justicia el protocolo de seguridad que existe y utiliza ese medio propio

la excusa que dan es que llegaba tarde y como llegaba tarde no tenía tiempo suficiente para aparcar todo eso es mentira porque ella no iba sola en el coche le podían haber dejado en la puerta principal haberse bajado y haber entrado perfectamente a dos manzanas del palacio de justicia hay un parking público

que estoy aparcando el coche luego utiliza una mentira para cargarse el protocolo de seguridad por estos hechos también hemos leído en esa publicación que usted ha sancionado a los dos agentes yo quiero conocer su opinión sobre estos hechos a mí me parecen escandalosos a mí me parecen una auténtica vergüenza pero quiero conocer su opinión porque igual yo soy muy sensible con estas cosas y esto es una cuestión común y normal o habitual quiero decir pues esos garajes no se usan mucho y están al servicio de cualquiera mañana me voy a san sebastián

su partido a una reunión en sabin etxea son muchos los que van no caben en el garaje de la sede oiga llamadita y guardan el coche en frente en el palacio

estos hechos son habituales estas violaciones de los protocolos de seguridad son habituales

pues no sé le he escuchado una novela un relato bueno supongo que usted conoce todos los hechos que ha relatado aquí no sé si es porque ha tenido

acceso directo o porque ha leído el diario o porque ha leído la publicación si la publicación está contrastada

de valoraciones en cualquier caso señor arbulo los planes de seguridad son eso planes de seguridad que deben cumplirse en su integridad en su integridad por tanto también los planes de seguridad de los palacios de justicia que en concreto son de marzo del dos mil doce

tanto para su funcionamiento habitual como los casos extraordinarios o excepcionales por tanto y respondiendo a su pregunta le diré que

mi punto de vista y además la exigencia debe ser que los planes de seguridad no deben incumplirse nunca nunca por tanto ni siquiera en los palacios de justicia no se debe acceder por lugares que no están previstos ni regulados para ello salvo

dentro de esas excepcionalidades que establece el propio plan de seguridad

autoridades competentes tanto de los propios palacios de justicia o de bien del departamento de seguridad
los planes de seguridad deben cumplirse siempre y en su integridad evidentemente también en los palacios de justicia eskerrik asko

me dice que me he inventado una novela no señora usted tiene un requerimiento

narrando una serie de hechos que han sido publicados en un medio de comunicación yo me he enterado por ese medio de comunicación si quiere le pido por escrito si existe ese informe si son

no si se deben cumplir los protocolos de seguridad y si es habitual que esas violaciones se produzcan son dos cuestiones muy sencillas y todavía le queda un ratito para subir aquí y decirme si es cierto o no es cierto lo que ha pasado o igual usted está convencida de que la señora múgica nunca entró en el palacio de justicia ni se le ha llamado a declarar allí

pero por favor conteste es que el ciento ochenta y cuatro del reglamento dice que yo pregunto y luego hay otro turno de réplica y dúplica no es yo pregunto y usted nos lee una novela o nos cuenta lo que le apetezca o habla de otro asunto no dice que se responde y que para eso hay unos tiempos
tasados y para eso está el reglamento muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko

señor ruiz de arbulo no tengo costumbre de andar a tiros y responder menos a tiros

apreciación y le sigo insistiendo en los palacios de justicia

con un plan propio de seguridad de obligado cumplimiento de obligado cumplimiento con sus mecanismos de autorización de control y de comunicación la actuación que provocó la apertura de un expediente por parte del juzgado decano de vitoria gasteiz expediente que se resolvió en agosto

en funciones del tribunal superior de justicia del país vasco sobre el uso irregular de una plaza de aparcamiento estableció que se trató de una

una resolución del juzgado estableció que se trató de una actuación irregular puesto que no había habido comunicación previa en la actuación prevista

competentes ni se dieron las condiciones de excepcionalidad que están recogidas en el reglamento y que así lo hubieran justificado en la parte que nos corresponde como digo a esa resolución del juzgado que fue comunicada a la viceconsejería de seguridad se procedió de acuerdo a lo que establece esa resolución se comunicó al jefe de división de investigación criminal

la resolución para que actuara en consecuencia a las personas afectadas se les recordó que deben cumplir con los protocolos de seguridad establecido y han sido como corresponde amonestadas por sus respectivos responsables y jefes de unidad por tanto atendiendo a la resolución del juzgado

baitigute el parlamento vasco considera que todavía hoy a pesar de los avances en esta materia queda camino por recorrer y la discriminación y los estereotipos de género siguen presentes en las pantallas medios impresos y publicidad

esta situación puede cambiar siempre y cuando todas las instituciones se comprometan y las niñas y jóvenes cuenten con apoyo para participar incidir construir y liderar

de las historias de niñas y niños en nuestra sociedad para lograr este fin

a mejorar el uso de la tecnología instrumental en particular la

y las comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer y b aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros

empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles pero sobre todo se hace imprescindible para hacer visible en algunos ámbitos mayores referentes mujeres que inspiren y empoderen a las niñas y jóvenes

es necesario que se creen espacios de participación y de toma de decisiones en los que las niñas y las jóvenes puedan participar sean visibles escuchadas y valoradas en igualdad